permítanme unos minutos para presentarles las bondades que en nuestra opinión tiene el proyecto de ley de juventud que el gobierno vasco ha presentado en esta cámara

en las últimas legislaturas lamento que eh bildu opte por la vía de la enmienda a la totalidad

animo a los grupos parlamentarios también a eh bildu a que continuemos trabajando en la búsqueda de acuerdos y les voy a confesar un secreto cuando este anteproyecto fue remitido por el consejo de gobierno al parlamento recibió un cariñoso mensaje de un ya exparlamentario de la oposición en aquel wasap

y que hubiera posibilitado en su opinión la mejora del texto preparado por el equipo de gobierno

les animo a seguir negociando para lograr un mayor consenso en torno a lo que será la primera ley de juventud de la comunidad autónoma de euskadi

desde esta tribuna tal y como lo he asegurado en privado nuestra voluntad para llegar

y es que para este gobierno la juventud es nuestro capital social y nos hemos comprometido a impulsar una política común y coordinada que ofrezca a la juventud vasca

lo vamos a abordar a través de la ley de juventud que he presentado ya en comisión parlamentaria en este debate es necesario recordar que euskadi carece de ley de juventud y hasta ahora

habían fracasado el objetivo de esta ley es establecer un marco normativo y competencial para desarrollar en el ámbito de la comunidad autónoma de euskadi nuestras políticas de juventud con esta ley se establece el marco normativo y competencial en la materia y se incorpora la perspectiva juvenil en el conjunto de las políticas públicas vascas de manera transversal

una ley que va a consolidar el trabajo de las instituciones vascas esta ley será el instrumento que dará mayor solidez al compromiso de los agentes políticos vascos con respecto a las políticas integrales de juventud la ley dará estabilidad a una forma de trabajo validada por el tiempo y asumida e impulsada por las instituciones

como decía insisto la ley vasca de juventud supone la consolidación de un gran esfuerzo de años de trabajo en la coordinación de políticas sectoriales

de una trayectoria validada por todas las instituciones vascas esta nueva ley vasca de juventud visualizará de manera estable y garantista

en la que están implicados los departamentos del gobierno vasco las tres diputaciones forales y eudel así como entidades juveniles y las propias personas jóvenes gainera

ditu como objetivos generales busca fijar políticas que favorezcan la autonomía y la emancipación de la juventud vasca es algo que venimos reiterando como objetivo de país también garantizar unos mínimos de calidad en la prestación de servicios y equipamientos destinados específicamente a la promoción de la condición juvenil y en tercer lugar ampliar los cauces de participación e interlocución de la juventud vasca con las instituciones

los profundos cambios sociales que en las últimas décadas han afectado a toda nuestra sociedad y a las personas jóvenes vascas en particular hacen imprescindible disponer de una ley vasca de juventud

esta ley se define en un contexto de transformación del mercado de trabajo y la vivienda que se traducen en tasas elevadas de desempleo o precariedad de empleo juvenil por un lado y por otro en altos precios de la vivienda tanto en propiedad como en alquiler muy alejados de los recursos de que dispone la gente joven esta realidad social dificulta también los proyectos de vida de las personas jóvenes

familiar de origen que no responde al deseo de las personas jóvenes

en los treinta coma dos años sin haber experimentado apenas variación alguna en una década el impacto de esta realidad en los proyectos de vida de las personas y sobre la sociedad vasca es algo que no nos podemos permitir tenemos la responsabilidad de facilitar sus proyectos de vida y la igualdad de oportunidades y necesitamos la contribución de las personas jóvenes por otro lado los procesos de socialización de niños y niñas adolescentes y jóvenes son hoy más complejos con situaciones más diversas y agentes de socialización padres y madres padres escuelas redes sociales nuevos roles

de un modo diverso hemos reflexionado a la hora de redactar esta ley por ejemplo sobre la realidad de los niños y niñas de los adolescentes de los jóvenes migrantes

hemos pensado a la hora de abordar esta ley en la relación entre familias y escuela en los colectivos más vulnerables de jóvenes o en el impacto de las redes sociales en los procesos de socialización y en el acceso de las y los niños a la información y determinados contenidos a edades muy tempranas

como resultado de una diversidad creciente de situaciones expectativas valores opciones y estilos de vida de las y los jóvenes se configura así un contexto de mayor complejidad de las transiciones vitales en consecuencia

asegurando el ejercicio efectivo de sus derechos y promoviendo su acceso a los medios productivos la inclusión social y el bienestar

de igualdad debe incorporar obviamente una creciente perspectiva de género estas políticas transversales deben permitir que puedan desplegar sus proyectos de vida y participar en la sociedad con un protagonismo real y prestando especial atención a quienes afrontan situaciones de especial dificultad

mediante actividades servicios y equipamientos específicos que acompañan los procesos de socialización crecientemente diversos y complejos

estos servicios deben orientar las actuaciones tanto al disfrute de cada etapa como a promover la maduración el aprendizaje y una autonomía creciente ya desde la infancia con el desarrollo de esta ley vamos a ordenar y reforzar los recursos

este sistema va a permitir impulsar la política transversal de juventud a través de instrumentos como la estrategia vasca de juventud o los órganos de coordinación interinstitucional e interdepartamental este sistema va a permitir impulsar la promoción juvenil mediante una red de responsabilidad pública con un catálogo definido de servicios y equipamientos específicos como les adelantaba la nueva ley se centra en tres grandes objetivos

a sus respectivos objetivos primero la emancipación y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas jóvenes que reconoce la normativa sectorial la ley entiende la emancipación en sentido amplio como desarrollo del propio proyecto de vida con autonomía y la emancipación

la ley apuesta por la consolidación normativa y el impulso de las políticas transversales con la coordinación interdepartamental e interinstitucional como medios la ley propone

dos nuevos instrumentos desde el gobierno vasco uno el órgano de coordinación interinstitucional en materia de juventud de euskadi y el segundo la comisión interdepartamental de juventud en segundo lugar la promoción infantil y juvenil la promoción del desarrollo de los y las niñas adolescentes y jóvenes y el disfrute de estas etapas de la vida en su doble dimensión

con valor y significado en sí misma como etapa en la que se sientan las bases de un futuro proyecto de vida autónoma

en tercer lugar la participación de las personas jóvenes asociadas y no asociadas como objetivo fundamental para responder a una necesidad de las personas jóvenes y también de la sociedad

la ley potencia el desarrollo de nuevas dinámicas participativas con las y los jóvenes con especial atención a la gobernanza y en particular al diseño ejecución y evaluación de la política transversal y de las actividades servicios y equipamientos específicos

la promoción de iniciativas juveniles para responder a sus necesidades e impulsar su protagonismo

de las principales obligaciones que se derivarían de la aprobación de esta ley y que constituyen elementos clave para su despliegue y efectividad

la nueva ley prevé la elaboración de la estrategia vasca de juventud estableciendo líneas de intervención interinstitucionales en función del contexto de cada momento

de la nueva ley supondrá el impulso de la planificación y evaluación de la política de juventud en las administraciones autonómica foral y local con carácter estratégico y anual

se deberán también poner en marcha la evaluación del impacto de todas las futuras normativas o planes en la juventud con carácter previo a su aprobación

se deberá tener en cuenta el impacto en la juventud en el seguimiento de la ejecución y la evaluación de las leyes reglamentos y planes a fin de aportar orientaciones y alegaciones el impulso de los servicios de apoyo establecidos por esta ley se concretará en las siguientes líneas de trabajo impulso y coordinación de la política de juventud estudios y documentación formación de las personas que trabajan profesionalmente o no con las personas jóvenes de las personas

y de miembros de asociaciones juveniles asesoría y consultoría incluido el voluntariado senior de asesoramiento recursos de apoyo como el observatorio vasco de la juventud

en cuanto al despliegue en materia de promoción infantil y juvenil a través de actividades servicios y equipamientos haremos

acometeremos el desarrollo de catálogo de servicios y equipamientos servicios

además la ley impulsará la dinamización de las redes de servicios información juvenil

en materia de participación la aprobación de la ley traerá el desarrollo de nuevos modelos de participación de las personas jóvenes asociadas y no asociadas y el refuerzo de la interlocución de la juventud con la administración de la comunidad autónoma de euskadi

también la capacitación de agentes que intervienen en las políticas y servicios de juventud en metodologías participativas y en cuanto a la coordinación interinstitucional e interdepartamental

interdepartamental de juventud de la administración de la comunidad autónoma de euskadi y el órgano de coordinación

también se deberá a organizar la coordinación en materia de juventud dentro de cada departamento de la administración de la comunidad autónoma y nombrar su representación ante la comisión interdepartamental

compromiso hoy debatimos como les decía una enmienda a la totalidad pero quiero seguir trasladando mi mano tendida para llegar a acuerdos amplios

y lo he trasladado a todos los grupos parlamentarios de esta cámara en las reuniones bilaterales que hemos mantenido con el objetivo de compartir impresiones y ver si podíamos encontrarnos en el camino confío en que estos acuerdos sean posibles porque la materia a los que se refiere son muy importantes para nuestro país mila

juventud futuro y frustración son palabras de la misma ecuación de pequeñas aprendimos que la matemática tiene mucho o todo de lógica pero a nosotras no nos entra en la cabeza que las evaluaciones

despejar todas las equis sin que se tengan en cuenta todas las variables que se dé por hecho nefasto para nosotras no entendemos la resignación en general pero menos en política institucional resignarnos a vivir peor que nuestras madres resignarnos a la precariedad vital a que la vida no valga nada a que nos contéis que todo va bien mientras la vida se hunde

eta baita gure jendarteak ere parece que la miseria de las jóvenes

solo son titulares morbosos nos da la sensación que ante los gritos de desesperación de la chavalería en esta ley de la selva donde se salva el que más tiene

hace oídos sordos otra vez no porque no lo oigan o no les interese simplemente porque se ha normalizado una barbaridad el que la juventud sea precaria

esa que cuentas a sus nietas al lado de la chimenea pero es que nosotras ni nietas

el momento el momento de cambiar de rumbo de plantarnos y marcar una hoja de ruta que se fundará en una ley de juventud para qué pues simplemente para no a toda una generación para que veamos que la política institucional vale para algo que los de los sillones verdes que salen en el teleberri con caras largas todas las semanas están con nosotras para que esta institución se haga cargo de lo que pasa en nuestras calles en nuestros barrios y en nuestras casas para que se cambien las vías de las personas

zerbait hobea eskaintzeko aukera errealak zeudela uste dugu o sea en estos momentos seguimos haciendo lo mismo para lo mismo

quiénes os han dicho que claro que la situación que vivimos es momentánea y tal y cual y que con una ley súper simple nos basta parece que se nos olvida que nuestro

y ahora nos toca legislar para las jóvenes con nosotras preguntando hablando debatiendo recogiendo todas las dudas existenciales de la juventud codo

y para que parezca que se hace algo entre preocuparse y ocuparse hay un gran salto no era el momento de ocuparse de hacer una ley sinsorga sino que era el momento

y diseñar una ley con y para las jóvenes badakizue ez dela nahikoa egungo egoerari aurre egiteko ekarri diguzuen legea motz

herri honekiko konpromisoagatik nos habéis demostrado

con la que estaba cayendo me esperaba algo un poquito mejor me esperaba una ley medianamente digna

pero es que no da ni margen porque es ineficaz nos parece que es ineficaz erakutsi diguzue legeak ez dituzuela gazteentzat egiten gazteok ez dugula zer esanik

eta erantzun egin behar diozue honi nahikoa delako qué pasa que no nos veis o más bien no queréis vernos no protestamos lo suficiente pues en los periódicos somos trending topic y el tema a estas alturas se canta solo parece que será

bi mila hogeiko urriak hamabi diario vascoko titularra la generación de los sueños rotos

la pandemia desnuda el drama del paro juvenil en euskadi igande honetako

discursos periódicos banqueros y trileros

te roban y te gritan y lo que no tienes también te lo quitan porque es indecente es indecente

buenos días a todos nosotros vamos a votar en contra

y lo vamos a hacer no por estar de acuerdo plenamente con la ley de juventud del gobierno vasco sino porque creemos que votará a favor de algo relacionado con la juventud que además venga de bildu

no podemos hacer otra cosa que no sea denunciar la idea corrupta que tienen de los jóvenes a los que solo utilizan como mero instrumento para ejercer la violencia política

cuestiones como la vida digna pues según los comportamientos que ustedes mismos amparan vida digna es aquella que se vive bajo vuestros propios preceptos algo inadmisible en una democracia moderna en donde conceptos como libertad reflexión y pensamiento crítico

dicho esto lo cierto es que desde vox creemos que se trata de una ley que no será excesivamente útil para los jóvenes vascos más bien la entendemos como un intento más de manipular de manipular el qué las mentes desde los poderes públicos limitando dirigiendo y conformando a los que comienzan a pensar por sí mismos a los que comienzan a ser críticos

me refiero por supuesto al adoctrinamiento generalizado por parte de los grandes políticos vascos de los grandes partidos políticos bildu y pnv y es que con esta enmienda la disputa está precisamente en ver en qué sentido adoctrinar a nuestros jóvenes

que pretenden inculcar en sus cerebros y ojo que digo porque basta con una lectura del proyecto para ver que no se especifica ni dan medidas concretas acerca de cómo paliar los problemas que viven los jóvenes sin duda tienen el diagnóstico y lo han hecho muy bien fomento de la emancipación

juvenil en conclusión tendremos más tiempo de hablar del asunto pero por supuesto décimos no a la enmienda de bildu

décimos sí a los jóvenes libres sin encorsetamientos ideológicos de ningún tipo

va bildu a decir a los jóvenes lo que deben hacer o pensar una cosa es

los mismos que además les han condenado a la precariedad eskerrik asko martínez andrea erantzunen txandan parte hartu nahi du

hainbat zuzenketa aurkeztu ditugu nos vamos a

de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo eh bildu al proyecto de ley de

y más en el contexto actual entendemos que este proyecto

sobre la juventud es necesaria y más en el contexto actual

en la juventud y en la juventud vasca con una tasa

con problemas de acceso a la vivienda y con dificultades para la emancipación sin duda la situación de los jóvenes vascos es enormemente delicada me refería a las tasas de desempleo juvenil y hay que recordar que si estamos

por debajo de la media de españa en el

aquí treinta y nueve coma uno estamos muy por detrás o detrás

donde esta cifra se sitúa en el treinta y uno coma setenta y cinco por ciento como digo en el primer trimestre

falta de oportunidades para muchos de nuestros jóvenes que tienen que irse a otros lugares y que luego deciden además no venir

sus periodos de formación nuestro apoyo

significa que estemos de acuerdo con el texto propuesto consideramos que es un texto excesivamente declarativo

se regulan contenidos concretos que se dejan sin duda a un momento posterior en ese sentido son numerosas las remisiones reglamentarias se deja para un momento posterior la regulación vía decreto de muchas cuestiones que deberían aparecer en el texto legal se trata a la vez de configurar un sistema

en donde se reconocen derechos subjetivos cuando en el sistema de juventud y en esta ley no se reconoce para nada ningún derecho

a la administración pública por tanto entendemos que no se puede hablar de un sistema vasco de juventud semejante al sistema vasco de servicios sociales

por otra parte la distribución y el deslinde competencial entre las diferentes administraciones públicas vascas implicadas en materia de juventud no queda a nuestro entender suficientemente clarificado e incluso se observa cierta intromisión en algunos

las diputaciones forales sin duda creemos que también una de las cuestiones en las que hay que hacer hincapié es erradicar los vestigios de odio en algunos jóvenes que desgraciadamente persisten no respetar a otros jóvenes por motivos ideológicos

recientemente desde luego nosotros condenamos todos ellos y lamentamos que a día de hoy algunos grupos lo mismo con representación en esta cámara por ello al considerar que este texto legal es manifiestamente mejorable hemos presentado un paquete de propuestas de enmiendas con el objeto de subsanar muchos de los aspectos que consideramos que son deficientes para configurar políticas verdaderas reales y efectivas

muchas de las personas y colectivos que han pasado por las comparecencias han repetido una y otra vez que hace falta una ley de juventud en euskadi pero una ley con garantías una ley con contenido y una ley con derechos para la juventud y con políticas públicas y presupuesto y con participación juvenil

vital precariedad laboral imposibilidad de acceder a una vivienda digna y expectativas de futuro truncadas la emancipación como un sueño o mejor dicho

bezala hemos dado muchas cifras en las últimas semanas pero hay un reciente informe que dice que el cincuenta por ciento de la gente joven en euskadi piensa que

que la actual y eso es un absoluto drama y no veo alarmas encendidas

el paro juvenil en el estado pero también aquí en euskadi es un problema estructural así hay que reconocerlo ser conscientes del tamaño de ese problema y poner medidas

como en el ministerio de trabajo con ambición las está abordando como por ejemplo con la nueva reforma laboral o con el nuevo plan de empleo juvenil pero para eso hay que darle ambición a un problema que es estructural y que afecta

bilakatuz hemos introducido un nuevo capítulo de derechos para la gente joven

de ingresos que permita el desarrollo de una vida digna derecho a participar pero sobre todo a influir en las políticas de juventud y derecho por supuesto a la emancipación juvenil una emancipación que como ya se ha dicho aquí en euskadi es muy tardía más de treinta años baina eskubideak inolako bermerik gabe ezartzea

reconocimiento garantía real mecanismos e instrumentos para hacerlos posibles y algunas de esas medidas mandatos y obligaciones que hemos introducido en nuestras enmiendas son

del acceso las garantías contra el fraude y contra la precariedad laboral la atención integral a las sexualidades políticas feministas y una perspectiva de género y reconocimiento de las diversidades la garantía de la no discriminación y la igualdad de oportunidades

diverso y que hay que hacer políticas que atiendan esa diversidad y

a la población vulnerabilizada y por supuesto lo que pensamos que es el gran reto que es el gran reto de la emancipación la creación de la red vasca para la emancipación juvenil

no es un nuevo nombre para llamarle al sistema vasco de juventud sino que tiene

ditugu tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud decía mafalda la profundización de la participación es fundamental en las enmiendas que hemos introducido por parte de nuestro grupo parlamentario señora artolazabal

solo es un ente eso no es participación juvenil dónde están los movimientos juveniles

que dice la enmienda a la totalidad que hoy nos ha traído aquí eh bildu y es que esta ley es muy necesaria pero es que no lo décimos ahora los socialistas vascos llevamos mucho tiempo diciendo

con un gobierno liderado por los socialistas se trajo un texto para su debate en esta cámara que fue rechazado por la mayoría de los grupos cada cual sabrá dónde estaba en aquel momento pero no queda ahí la cosa ha sido empeño también de los socialistas que dentro del acuerdo de gobierno de coalición partido socialista de euskadi y partido nacionalista vasco ambos partidos acordáramos la incorporación

a un proyecto de ley de juventud dentro de nuestro acuerdo de gobierno y ese es el verdadero empeño y el verdadero compromiso que mostramos ambos partidos los que sustentamos a este

la enmienda a la totalidad a la ley de juventud señalaba la necesidad de dar respuestas a los retos a los que nos enfrentamos y especialmente a los retos que les conciernen

una enmienda a la totalidad a una ley que precisamente lo que pretende es colaborar

a esos retos de futuro que tiene la juventud vasca para tener un proyecto de futuro que le dé garantía una ley que lo que pretende es precisamente consolidar los derechos de la juventud vasca no es renunciar a la presentación de enmiendas parciales que puedan mejorar esa ley la respuesta no es a ese diálogo que sin duda puede derivar en una mejora del texto presentado la respuesta a los retos de futuro que tiene la juventud vasca precisamente es la propia ley que sin duda podrá mejorarse algo a lo que

porque han preferido criticar al gobierno que hacerle aportaciones de mejora han renunciado al diálogo porque en eso ustedes se sienten mucho más cómodos

que en la colaboración prefieren la confrontación a la propuesta el contraste de ideas para intentar mejorar un texto que como decía es fundamental para que la juventud vasca pueda afrontar con garantías los retos que tiene

es eso la respuesta es la ley es la consolidación de los derechos para los jóvenes y las jóvenes

las políticas que impulsa este gobierno ojo y las políticas que también se pueden proponer

de las iniciativas de impulso político que la oposición pueda traer a esta cámara es la consolidación de derechos como decía a través de esta ley y ustedes

es esta enmienda a la totalidad lo cierto es que han tenido dos legislaturas para traer a esta cámara algo que ustedes conciben como imprescindible

solo tenemos una enmienda a la totalidad como receta para resolver unos problemas que ya están entre nosotros y de alguna manera en lo sucesivo cuando ustedes salgan a criticarnos por haber aprobado este texto nos estarán dando la oportunidad de decirles que ustedes renunciaron a mejorarlo

legislativa en la acción política es tan importante hacer oposición como tener una actitud propositiva y desde luego en ustedes y en esta materia concreta
no la hemos encontrado desde el minuto uno eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

que el día a día es capaz de enterrar hasta las mejores intenciones pero si nos limitamos a pasar página y no averiguar

el aviso de la oms del veintitrés de enero del veinte a todos los gobiernos del mundo para que se prepararan o que falló en la reiterada recomendación

empezando en este caso por la comunidad científica pero siguiendo también con los sindicatos empresarios con la red de protección social por qué ni tan siquiera se contó con este parlamento pues si no somos capaces de hacer un ejercicio crítico

sino para reparar y aprender de lo que no hicimos si no somos capaces de eso entonces tampoco podremos extrañarnos de la desafección ciudadana o de que cobren fuerza tesis políticas populistas triunfalistas o directamente

adostasunak eraikiz ez goitik behera ezarriak ez kalkulu elektoral hutsak baldintzatutakoak lo vengo repitiendo desde el inicio de la actual crisis es preciso

por delante y el momento creo que es ahora escuchaba escuchaba el pasado martes

que los presupuestos de dos mil veintidós afrontarán la situación de crisis derivada de la covid diecinueve y sus consecuencias económicas y sociales además de atender a los grandes objetivos de la acción de gobierno hau da

a recuperar el modelo de crecimiento económico anterior

intensivo globalizado y el cual incorpora muchos componentes que explican los orígenes de esta pandemia y otras que pueden acecharnos en el futuro

precarizados con pensionistas que viven angustiados

una reflexión del consultorio internacional de desarrollo económico local e investigador asociado del instituto vasco de competitividad

que limitarse únicamente a informar no es participar informar a los actores de este país

no es suficiente cuando se habla de participar se trata de generar espacios de confianza para generar esfuerzo e ilusión colectivos y sin esa participación

de la agenda de reconstrucción económica social ambiental sanitaria e institucional que precisa este país herri honen zati honen etorkizuna pentsatzeaz

en definitiva lo que les propongo es un profundo cambio una nueva forma de pensar y hacer las cosas para que los resultados también sean distintos una forma de hacer y pensar basada en la cooperación y no en la imposición en aceptar que tenemos nuestras razones pero que los demás también tienen las suyas y creo que podemos hacerlo

lección podemos afrontar el futuro con mejores perspectivas hacerlo como una nación que cree en sus propias capacidades y en su futuro

con una juventud que ya se ha explicado anteriormente

se encuentra con generaciones de personas que temen por suspensiones podemos cambiar de modelo e intentarlo y en todo caso desde luego está en nuestras manos eta horrekin batera hausnartu beharko dugu gure gaitasunez gure erremintez

las capacidades que sí tenemos que sí tiene este país que sí tiene esta parte del país hemos oído términos como mando único mando delegado estado de alarma cogobernanza

sino que el modelo político y jurídico por el que nos regimos no es el que necesitamos ni de lejos porque el estado al que pertenecemos actúa como freno

profundamente sobre ello más allá de preparar algunas leyes deprisa para salir del paso euskal herriak euskal herriaren zati honek badu gaitasuna

egun on guztioi nos dice la señora iriarte aprender de la pandemia para construir el futuro

en eso sí estamos de acuerdo aunque me ha parecido

y a diferencia de lo que encuentro en el texto en la parte dispositiva desde luego en el texto de la iniciativa que nos presenta pues de alguna manera parece que se nos transmite

ese aprendizaje de la pandemia para construir el futuro solo se puede llevar a cabo con el proyecto de la independencia que en este caso bueno nosotros no compartimos aunque sí compartimos buena parte de lo que ha expuesto la señora iriarte antes de llegar a ese punto nosotros entendemos y así lo entendíamos cuando hemos visto la iniciativa que estamos ante un debate que va más allá de las medidas concretas de respuesta a la pandemia

un debate que va más allá de la cuestionable gestión que el gobierno ha realizado de la pandemia nosotros

no queremos conformarnos con decir como algunas veces escuchamos algunas voces

no estábamos preparados y preparadas para ella pero eso tiene que ver con el modelo que teníamos y desde luego no estamos de acuerdo con

básicamente vienen a decir que la respuesta del sistema ha sido maravillosa la respuesta de los gobiernos durante la pandemia es una cosa desde luego nosotros estamos satisfechos con la respuesta del gobierno del estado del que formamos parte porque

dirección pero la respuesta de los gobiernos durante la pandemia es una cosa y el modelo que tenemos y cómo ese modelo ha respondido a la pandemia es otra cosa tanto aquí como en el conjunto del estado entendemos por lo tanto que estamos ante un debate de fondo y nosotros sí recogemos el guante porque sí pensamos que es necesario

y lo hago ahora con nuestra intervención planteamos nuestra visión sobre ese debate de fondo

los retos de país tan utilizada y ese debate desde luego no se puede valorar en estos momentos sin observar lo que ha supuesto la pandemia sin valorar cómo y por qué ha impactado como ha impactado en las condiciones

en nuestra opinión el sistema ya había mostrado su incapacidad para garantizar una vida digna a mayorías sociales y había mostrado su enorme fragilidad con anterioridad

lo que ha provocado muchas de las consecuencias nefastas en forma de determinada crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria

en las últimas décadas es lo que nos ha provocado un grave problema de seguridad y una insuficiente capacidad de respuesta para garantizar la seguridad vital y material de todas las personas la actual crisis pandémica

a euskadi y sobre todo a su modelo económico y productivo y a sus servicios públicos delante

décadas de un modelo de externalizaciones privatizaciones de un determinado desmantelamiento de los servicios públicos de una transferencia de capital público al sector

y años de políticas fiscales al servicio preferente de quienes más tienen han tenido y están teniendo consecuencias importantes para buena parte de la población vasca evitar la repetición de pandemias globales es algo que solo puede lograrse

con una apuesta por la investigación por el desarrollo y la innovación firmes pero impulsadas por intereses de salud pública y no por intereses comerciales y de negocio

o esta pandemia pero preparar a nuestro país sus instituciones y su economía para que no vuelvan a repetirse crisis

es responsabilidad nuestra y es responsabilidad de las administraciones vascas y requiere del mismo liderazgo y protagonismo de lo común es decir de lo público

era ese nosotros lo hemos dicho muchas veces antes durante y después de la pandemia adelgazamiento de lo público economía y producción en manos de los mercados exclusivamente fiscalidad injusta

y no ser capaz de aguantar una crisis grave e imprevista no ser capaz de resolver los problemas materiales reales de condiciones de vida

por eso pensamos que este panorama hace más siempre imprescindible ahora ese debate sobre el modelo que tenemos abordarlo ahora debate que debe articularse sobre el fortalecimiento de lo público la generalización

y su obligatoria garantía de cumplimiento y respeto por parte de las administraciones públicas la recuperación de la capacidad de dirección de la economía

que garantice la soberanía económica del país la conclusión a la que llega a nuestro grupo

es necesario un cambio de modelo con la llegada del covid el modelo ha sufrido un duro golpe y nos sitúa ante una encrucijada en la que por primera vez y esto es bueno por primera vez en mucho tiempo la idea mayoritaria en la sociedad es una voluntad decidida de apostar por lo común

porque se ha demostrado en esta pandemia que es lo común y por lo tanto lo público lo que sin duda da garantías y confianza a la mayoría de la gente frente a lo individual

insuficiente e inseguro para garantizar la vida digna a las personas en este sentido pensamos que hoy es más posible que antes conseguir las políticas neoliberales conseguir un incremento de la intervención pública en la planificación y dirección de la economía

y poner en marcha una política presupuestaria expansiva y una política fiscal progresiva que grave eficazmente a las rentas del capital

que no se puede dejar exclusivamente en el ámbito institucional y al albur de los gobiernos estos debates de fondo por eso nosotros lo que planteamos en nuestra enmienda le instamos al gobierno en este caso a promover

sindicales y económicos del país pero no para un debate

un debate para el fortalecimiento de los servicios públicos para la garantía y extensión de los derechos sociales y laborales para la transformación del modelo socioeconómico y productivo

equiparable al contexto europeo para convertir entonces sí esta crisis sin precedentes en una oportunidad de transformación del país desde el liderazgo público

económica y fiscal para garantizar la creación de riqueza y su justa redistribución de forma que avancemos en cambiar las bases de nuestro modelo económico una amplia inversión pública imprescindible y para conseguirla necesitamos medidas fiscales estructurales no podemos conformarnos con esperar la llegada de los fondos europeos una reforma fiscal que recupere el carácter progresivo de los impuestos especialmente de los impuestos al capital aprovechando el serio cuestionamiento que en estos momentos existe

sobre las políticas de recortes y privatizaciones que se realizaron en el pasado por eso nosotros proponemos también en nuestra

instar al gobierno vasco a trabajar en favor del interés general y colectivo anteponiendo lo público al interés particular sobre unos principios concretos cinco principios

utilizando mecanismos de reversión de lo público de elementos privatizados y externalizados un sector público potente para unos

que no es realidad porque necesita políticas decididas para hacerlo realidad una de ellas fundamental la política fiscal iniciativa pública en la actividad económica

y también los económicos que sabemos que no se cumplen y finalmente transformación y nueva organización social del sistema de cuidados reconocimiento como derecho su profesionalización y con el horizonte de un sistema público de cuidados porque otra de las grandes cosas que nos ha enseñado la pandemia es que sin los cuidados no hay no hay sostenibilidad de la vida y estos siguen recayendo en las mujeres siguen recayendo en el ámbito privado y en aquello que se ofrece desde servicios públicos

absolutamente privatizado todas estas cuestiones

todas estas cuestiones las instituciones vascas tienen competencia y por lo tanto podemos abordar ese cambio de modelo y eso es lo que nosotros proponemos al hilo de este debate

cuando nos habla de una hoja de ruta clara para no dejar a nadie atrás de luchar contra la precariedad de defender los servicios públicos un nuevo modelo de cuidados combatir la emergencia climática

me parece muy bien y lo comparto pero eso también se llama programa de gobierno se llama iniciativa legislativa que se debate todos los jueves en este parlamento y con la que ustedes pues bueno pues no suelen ser muy corresponsables lógicamente porque su papel de oposición de alguna manera

ahí pues bueno no hay estrategia de país o no hay necesidad de acuerdos plurales en muchas de las cuestiones que traemos o se traen a debate

a mí me parece muy interesante lo de los expertos independientes y el ejercicio colectivo para definir propuestas a largo plazo

porque creo que es una aportación necesaria que enriquece además en cierta medida la labor del propio gobierno y yo como decía es algo que lo vemos

además lo ponemos en práctica en nuestro día a día en aquellos departamentos que lideramos es entre otras cosas una máxima que viene utilizando el partido socialista en los diferentes gobiernos y cabe recordar es lo que ha hecho

sin gran acogida por parte de la oposición dicho sea de paso y es que lo hicimos también los socialistas vascos en la anterior crisis

para asuntos socioeconómicos del que por cierto salieron documentos y debates muy valiosos sobre el reto demográfico

sobre los sectores estratégicos para la economía vasca sobre la reforma fiscal reflexiones que por cierto fueron menospreciadas también en su momento y que cada año que pasa se ven más pertinentes

aquellas reflexiones eran sin duda muy acertadas entonces cuando usted habla de elevar el debate político de mirar más allá de contar con expertos para definir una estrategia de país

lo que hemos venido haciendo y creo que es muy bueno que ustedes se sumen también a esa visión a esa

una práctica que por otra parte como le decía se ha venido realizando de la mano de los socialistas el problema de su iniciativa es que todas esas buenas intenciones

de su moción y entiendo que es su receta para cualquier problema que hay un problema económico más soberanía cómo defendemos los derechos laborales

cómo reforzamos los servicios públicos más soberanía y claro entendemos que con un marco tan acotado es difícil que el resto o que por lo menos algunos partidos encontremos puntos de encuentro el otro día citó en el pleno de control que

el libro blanco contra el covid el documento impulsado por una serie de expertos de diferentes ramas para analizar las políticas llevadas a cabo frente a la pandemia y plantearon una serie de recomendaciones

y muy válidas pero es cierto que en ese documento en ningún momento se hace mención alguna al nuevo estatus ninguna

todas las propuestas referidas al marco normativo parten del reconocimiento a la legalidad vigente y se limitan a recomendar posibles reformas incluso hace una valoración de urgencia porque les pilló

de la pandemia que se está actualmente debatiendo pero claro esa parte probablemente a usted pues no le interese tanto porque usted quizá lo que quiera sea debatir también sobre otras cosas lo que viene en el punto cuarto de su propuesta precisamente y ahí como bien sabe

con nosotros y ahí no nos van a encontrar porque no es nuestro modelo y porque saben que tenemos diferencias profundas al respecto pero no nos van a encontrar además porque no tiene nada que ver con los problemas que hoy usted misma ha planteado aquí y mire ya

y a su primera nota a pie de página la primera cuando explica que para algunos artículos han utilizado como referencia a la comunidad autónoma vasca y para otros la comunidad foral de navarra

son de similar aplicabilidad para cualquier parte del territorio en definitiva que esto no va de menos

y que en vez de aprovechar el viaje para cuestiones para cuestionar el marco vigente lo que tenemos que hacer es exprimir al máximo sus potencialidades buscar la colaboración

a través de las conferencias sectoriales del consejo interterritorial de salud de las conferencias de presidentes

corresponsabilidad similar de compartir experiencias y de debatir conjuntamente entre todas las instituciones lógicamente con sus conflictos

pero creo que con una muestra de vocación federal que responde también a la pluralidad de este país y que asemeja mucho al modelo que nosotros particularmente queremos para este país y cogobernanza también europea que es la que está permitiendo avanzar

hacia el objetivo deseado el setenta por ciento en verano y la puesta en marcha de unos fondos que sin precedentes que van a marcar el camino de la recuperación europea y a partir de ahí

trabajos de prospectiva asesoramiento de expertos acción de gobierno coordinada con otras instituciones y acordada con el mayor número de agentes políticos económicos y sociales de este país si un desafío ha requerido en los últimos años la definición de una estrategia de país sin duda ha sido esta pandemia pero si a lo que vienen aquí es a hablar de nuevo de la consulta que rompa la legalidad que nos divida a los vascos y nos asome al abismo por el que ya se ha despeñado cataluña

sistemikoa aplikatzeko vivimos una época la pandemia que multiplica las posibilidades de la crítica sistémica hor dago gakoa

buenos días señora presidenta consejero señorías señora

de lo ocurrido de los problemas de las disfunciones de los errores y de lo que ha pasado pero entendemos que eso no es la clave auténtica de su moción para

funcionando en las claves tradicionales del nacionalismo en este caso se adereza con una necesidad de reflexión

nivel y de ejercicio colectivo pero lo que busca es presionar con las claves continuistas que hasta ahora no han funcionado

avances en la relación con las estructuras que ya tenemos y eso es lo que pretende de alguna manera entendemos nosotros esta iniciativa yo creo que el ejercicio colectivo que usted reclama lo hace la sociedad todos los días cada uno en su sitio y con su responsabilidad nosotros el grupo popular ciudadanos desde nuestro papel de oposición

y supongo que usted también pensará que lo hace igual que lo hacen instituciones colectivos personas pero su iniciativa va un poco más allá

una pandemia como es un momento disruptivo

nuevo estatus es decir el nuevo estatus

permanente si estamos en momentos de desarrollo nuevo estatus

nuevo estatus si estamos en estabilidad nuevo estatus

la solución nacionalista para todo y la clave de que hay que dividir de nuevo a la sociedad y si se puede al gobierno en este caso no sé si casa muy bien señora iriarte pedir un ejercicio colectivo una creación de un foro de análisis y transformación y a la vez tratar de apuntalar las experiencias pasadas de búsqueda

construir un foro de análisis estratégico de retos y a la vez seguir propiciando la división política la parlamentaria incluso la del propio gobierno no se sabe muy bien lo que pide esta iniciativa

objetivo completo en relación con los retos del futuro pero sí se sabe que reclama reforma del instrumento político que más nos ha unido a los vascos

lo más consistente de su iniciativa es que hay que superarlo y eso es

generar problemas no arreglarlos o sea lo contrario

por ello para mi grupo oponernos a esta iniciativa nos deja bastante tranquilos primero porque entendemos que no es necesario

y por otro porque entendemos además que existen elementos de reflexión de seguridad de reforma que ya están funcionando de alguna manera lo pueden hacer mejor y que habrá que apoyar y que hay que apoyar entre todos nosotros también tenemos un papel clave en ese sentido son los instrumentos que existen

en los que tenemos que seguir confiando existen

y ahí está la unión europea en pleno proceso de ayudas a los estados con sus planes de recuperación y resiliencia esos sí que van a ser auténticos elementos de reflexión y de análisis y de proyección a futuro o en el proceso abierto

de europa hay ahí en esos marcos están las claves necesarias para nuestro futuro y estos son elementos de seguridad política y democrática suficientes para enmarcar las conclusiones de lo ocurrido y proceder

también las claves para consolidar lo que tenemos para perfeccionarlo

ahí están los auténticos retos estratégicos de futuro desde nuestro punto de vista eso que pide la moción como oportunidad de transformación ya se enmarca

de sus estados si se vinculan al mismo entendemos que el nuestro sí lo hará y también en otros ámbitos de intervención y decisión la actuación de los gobiernos de los parlamentos

del consejo interterritorial del sistema nacional de salud con sus errores pero ahí están los elementos sobre los que tenemos que jugar no hay que inventar más cosas es decir algunas de estas cuestiones no han funcionado bien tendrán que hacerlo

retos de futuro en todo este entramado se encuentran hoy los expertos

ya estarán sacando conclusiones de lo ocurrido y de las alternativas por las que debemos optar por eso nosotros lo que tenemos que hacer es exigir a los gobiernos responsabilidad visión de futuro es decir altura de miras en relación con estas cuestiones

trabajando sin que tengan formar parte de un supuesto foro o núcleo de trabajo

de una iniciativa como la suya usted con esta iniciativa nos está proponiendo la creación de una especie de órgano nuevo de consejo de senado ad hoc

con lo que tenemos pero lo tenemos ha puesto usted algunos ejemplos en relación con políticas que deben ser mejoradas que deben ser asumidas en las que hay que plantear esos proyectos estratégicos

pero también con la normalidad del trabajo que pueden llevar a cabo las instituciones y los ámbitos de decisión y con los mecanismos además que tenemos

tenemos vocación de seguir reflexionando trabajando y actuando en el control al gobierno o en el impulso de su labor

o en la aportación de ideas y de propuestas que desde luego es lo que nos corresponde oyendo también a la sociedad oyendo a los expertos a las sociedades científicas a esas claves que nosotros tenemos que traer aquí también como voz a este parlamento

el primero que señala el momento disruptivo que hemos vivido y vivimos y eso es verdad y entendemos

encarando los retos eso entendemos que se puede hacer y que se debe de hacer

que falle pero se debe de hacer y hay elementos e instrumentos para hacerlo

en esta institución o en otras se trabaja todos los días en esta que estamos en el parlamento vasco nosotros entendemos y seguimos

un elemento fundamental central en la vida alrededor del gobierno alrededor de la sociedad y nosotros entendemos que desde aquí se puede ir trabajando en las claves que usted piensa de retos y de planeamiento estratégico elaborar propuestas comunes consensuar medidas es propio de las instituciones eso es lo que tenemos que hacer aquí no con el concurso de los expertos desde luego y agentes pero señora iriarte los mecanismos entendemos que ya

y debemos utilizarlos y las administraciones lo deben utilizar en el tercer punto habla usted de la identificación de modelos de gobernanza está claro que las

desconcertantes muchas de ellas cuestionables también en estos meses pasados creo que la administración para lo que está es para dar confianza dar seguridad para dar certeza a los ciudadanos y esto ha fallado en ocasiones está bien claro que

y desde luego eso hay que superarlo también pero también tenemos los mecanismos para ello demasiadas improvisaciones faltas de entendimiento

pero esas situaciones vuelvo a decir ya identificadas deben ser claves de acuerdo y de colaboración política

problemas de gobernanza y en eso este gobierno el gobierno de españa debe de corregir

porque eso ha llegado a la sociedad y en el punto cuarto con el nuevo estatus en el punto cuarto de su moción con el nuevo estatus es la clave de la iniciativa

es el punto cuatro de esa iniciativa yo creo que lo demás

en torno a ese propósito mire yo no creo que el nuevo estatus forme parte de la superación de nuestros problemas actuales y si es un reto igual es un reto pero lo es

los nacionalistas no para todos no para el conjunto está claro acabo que lo necesario hoy es un marco de leal y constructiva colaboración entre todos los agentes nombrados institucionales sociales económicos científicos cada uno en su sitio para dar respuesta

nosotros en este parlamento sin generar problemas a los ciudadanos y controlando la acción del gobierno muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

el tono y la consideración que hace de las intervenciones de en nuestro caso del portavoz de nuestro grupo

a la independencia es sencillamente porque usted ha hecho referencia a ella en su primera intervención pero también como antes le he dicho en su iniciativa concreta escrita lo que se va a votar

no hacen referencia a ella pero ustedes en su discurso

se desprende que de alguna manera ese cambio de modelo en lo que

ha dicho que también comparte buena parte de lo que nosotros hemos expuesto aquí que ese cambio de modelo de alguna manera parece que no puede producirse sin el avance en esa

nosotros estamos convencidos más allá de que siempre hemos respetado el derecho legítimo a defender cualquier posición política

desde hace casi cien años en el caso de mi partido pensamos que los cambios de modelo que necesitamos en euskadi y que pensamos que la pandemia ha puesto de manera más evidente sobre la mesa que lo necesitamos al menos desde la visión de nuestro grupo

perfectamente con las herramientas y con las competencias que tenemos sí nosotros queremos

y algunas competencias más pero se puede hacer perfectamente las cuestiones

en nuestra enmienda y así lo he dicho también las instituciones vascas son perfectamente competentes las limitaciones que tenemos no tienen tanto que ver con el nivel competencial entre instituciones en este sentido sino con el propio modelo y sistema en el que estamos

el sistema capitalista el sistema que llaman de libre muchos de los problemas de soberanía la soberanía es una cosa diferente a la independencia o a la creación o no de un estado propio

con ese modelo económico social del capitalismo

que con la estructura de estado y de reparto competencial que tenemos por eso nosotros pensamos que la parte interesante de su iniciativa

es el hecho de abordar de manera colectiva un debate sobre el futuro de país en ese momento en este momento que ustedes califican de

legítimo y me quisiera dirigir aquí al señor egibar no se ha referido usted a nosotros en ese sentido pero no se trataría en el caso desde luego de mi coalición de aprovechar una crisis

con el modelo sino de pensar cómo ha afectado la crisis

porque es evidente que esta crisis ha tenido un impacto sobre el modelo que tenemos este es un ejercicio que de alguna manera por ejemplo en el congreso de los diputados

la mesa o comisión de reconstrucción que habrá llegado hasta donde haya llegado pero en la que sí hubo

y pensamos nosotros sí pensamos que este es un debate que es interesante y en ese sentido sí recogemos el guante y sí sería interesante

desde luego luego cada grupo lógicamente defenderá cuáles son

por eso hemos llegado a ese grado de concreción al que se refería también la señora iriarte porque si hubiese sido para hacer un acuerdo

para hacer ese debate pues desde luego nosotros ahí nos dejamos fuera todos esos posicionamientos políticos que ya los llevaremos a ese espacio pero era evidente

sería muy interesante que después de una crisis pandémica como la que hemos vivido sí que hubiera ese ejercicio de debate colectivo sobre el futuro del país y que cada uno lo llame como quiera reconstrucción o como quieran a mí me da igual el término sí me parece interesante y a mi grupo esa parte

sería para cambiar el modelo que tiene unas profundas debilidades y para defender también aquellas cosas del modelo que sí creemos que son buenas y que han respondido bien

el núcleo de los servicios públicos en la parte que han respondido bien eskerrik asko

de autocomplacencia yo creo que es una enmienda que refleja la realidad

de gobiernos que han colaborado que han aplicado la cogobernanza la colaboración interinstitucional y que a través del diálogo pues bueno han conseguido

a una situación tremendamente delicada y creo que han sido capaces de adaptarse a una realidad que desde luego

de las palabras a los hechos y yo creo que precisamente los socialistas si algo hemos hecho ha sido aplicar esos principios de diálogo de colaboración de búsqueda de acuerdos en todos los ámbitos y entre gobiernos especialmente en las reuniones interterritoriales en las conferencias de presidentes colaborando entre instituciones para sacar el mayor rendimiento posible a los fondos europeos y también

con otros agentes sociales y políticos de este país y hablando también con expertos en todo momento para aplicar

que en cada momento entendíamos que eran las más adecuadas para hacer

a nosotros en una situación como esta no nos encontrará en un debate que creo

decía el porcentaje de personas que estarían en desacuerdo con la independencia tiene la mayor subida desde que hay registros se sitúa en un cuarenta y uno por ciento

que tanto les gusta muchas veces poner encima de la mesa con el porcentaje de personas que se define tan vasca como española y algo tendrá que ver esto

nuestra salud y las cosas que verdaderamente importan a la ciudadanía como puede ser el empleo la vivienda etcétera etcétera pero la ciudadanía no quiere meterse en otro tipo

en este tiempo cuanto más claro ha visto la necesidad de unos gobiernos fuertes

a la pandemia nos está diciendo que nos dejemos de líos de consultas y de la búsqueda de otros modelos que desde luego lo único que va va a ser el enfrentamiento y cuando usted pone encima de la mesa debates como el derecho

yo le digo que desde luego los socialistas vascos nunca vamos a eludir ningún debate nosotros estaremos en todos los debates porque es nuestro compromiso con esta sociedad y con la ciudadanía que nos ha situado en esta cámara pero desde luego si me pregunta por la reforma del estatuto yo le diré sí desde luego sin duda pero basado en dos pilares primero el respeto a la legalidad es decir los socialistas vascos no vamos a participar nunca

el respeto a la pluralidad a la diversidad que convive en euskadi que creo que también es una seña de identidad de nuestro país nosotros no queremos debates que se sitúen exclusivamente

que se alejen también de ese derecho a decidir en la exclusión de una parte de la sociedad vasca nosotros queremos que esos debates susciten acuerdos amplios plurales

euskadi que es una tierra plural diversa en el que convivimos personas que pensamos muy diferente es un debate que haga que todos consigamos un marco de convivencia que sea sólido y que la ciudadanía vasca no lo vea como un acuerdo entre partidos sino que más allá de eso lo sientan suyo

que tenemos los vascos y ese debate tiene que servir también por supuesto para blindar nuestras competencias y tiene que servir por supuesto para hacer fortalecer nuestros servicios públicos frente a cualquier tentativa que lo que quiera traernos sean recortes de derechos sociales

le digo más lo que tiene que pretender ese nuevo estatuto tiene que ser el reconocimiento y la incorporación en dicho estatuto de todos los derechos sociales que hemos venido conquistando durante los últimos años como el de la rgi como el derecho subjetivo a una vivienda como tantos y tantos derechos que se han debatido en esta cámara que son conquistas sociales que son conquistas que han tenido

son parte muy importante y representativa de lo que somos como sociedad de lo que representamos como sociedad y sobre todo como un marco de convivencia que es el que tiene que garantizar

aipatu da ere la asociación de directores y gerentes de servicios sociales

con eficacia y eficiencia nola cómo elkarlanean

zertarako pertsonen eskubideak zaintzeko preservando los derechos de las personas todos los derechos de las personas y en primer lugar los económicos y sociales nola

reforzando los servicios públicos y ya pasando a lo que es este debate

también tiene que ver con nuestro fondo competencial y preservar también nuestras competencias exclusivas que el afán recentralizador

es impresionante y ya que se hablaba del estatus

quiero recordar que entre los puntos aprobados aprobados por la ponencia de autogobierno de este parlamento para el nuevo estatus hay uno

identificación y delimitación de competencias en referencia a este debate que hemos tenido el estado de alarma hasta qué punto los derechos fundamentales pueden ser regulados por otras instancias diferentes a los poderes del estado

será titular de los derechos fundamentales establecidos en el nuevo estatus político vasco la constitución española el convenio europeo de derechos humanos la carta de los derechos fundamentales de la ue así como los derivados de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se hayan suscrito y ratificado por el estado español y las instituciones vascas

limitando para ello la capacidad de incidencia de la normativa orgánica estatal que deberá ceñirse a legislar un contenido mínimo común normativo pactado sin impedir ni condicionar desarrollos más completos y garantistas por parte de las instituciones vascas

de mil batallas que hemos tenido entre otras cosas con un nuevo estatus que no estamos hablando de cosas evanescentes sino que estamos hablando también del orden material de la política de las cosas

vivimos tiempos complejos como país y la responsabilidad que tenemos ante el pueblo vasco nos exige a todos y todas

presidenta brevemente desde el escaño dos cuestiones para fijar la posición también en relación con las dos enmiendas que se han presentado

forma parte de la obsesión la obsesión de que todo lo que nos rodea es neoliberal y destructor de lo público precisamente al revés cuando cada vez cada

legislatura que pasa lo que vemos en la mayoría de las instituciones y de los gobiernos

y siempre con esa matraca de la privatización y de lo privado y de la desconfianza hacia la colaboración público privada que es muy sana y que además es enriquecedora de la sociedad

elkarrekin podemos en estos temas pues desde luego no podemos compartir y bueno y que vamos a decir

de que alguna enmienda era un bajonazo pues bueno sigue siendo lo mismo las enmiendas de totalidad que apoyan el gobierno en relación con lo que ha pasado es una

autocomplaciente la ausencia de crítica es permanente no solamente

no sea tan procedente pero en cualquier discurso por eso mismo está bien claro que ha habido muchos fallos

autocomplaciente y decir que todo ha estado positivamente está claro que

para concluir de acuerdo que tenemos retos de futuro

trabajar duro pero nuevo estatus es crear más problemas a los ciudadanos ponerlo de manifiesto traerlo aquí que vuelva a ser ámbito de confrontación de debate es generar más problemas a los ciudadanos

vasco en relación con qué opinamos los vascos sobre la independencia y nunca había habido cotas tan bajas o sea que en ese sentido en estos momentos donde usted

la generación el traer aquí el debate del nuevo estatus sería un paso atrás sería dar más problemas y desde luego nosotros

señorías por qué estamos aquí hoy hoy estamos aquí para votar una moción consecuencia de una interpelación a propósito de una situación de un caso muy preocupante que nos ha afectado a toda la sociedad económicamente en nuestra comunidad

consultoras no estamos aquí por una sanción de un órgano administrativo a unas empresas eso es un tema que ha sido sancionado

no estamos aquí para dilucidar una responsabilidad penal o una responsabilidad administrativa

para analizar para debatir cuál es el papel que tiene que tener el gobierno ante una situación de estas características lo gravísimo de los hechos lo gravísimo de los hechos que siembra muchas dudas y sobre todo siembra muchas dudas sobre lo que es el sistema de contratación pública

hacen que la credibilidad del propio sistema de contratación quede muy comprometido quede muy comprometido la contratación pública señorías como ya saben todos es importantísimo la contratación pública supone un gasto aproximado en el estado de más o menos el diez por ciento del pib y aproximadamente

fundamental de la contratación pública dependen los servicios públicos

servicios que se prestan también complementariamente en la sanidad en la educación en todo en todo por eso creemos que es importantísimo

sea tratada en este parlamento porque lo que venimos hoy aquí es simplemente a pedirle al gobierno estamos aquí para pedirle al gobierno que ejerza su papel institucional que ejerza el papel institucional de gobierno no se está aquí para pedir responsabilidad penal administrativa civil extracontractual a nadie se está para pedirle al gobierno

que es distinta de la responsabilidad jurídica de la responsabilidad que podría ser civil su responsabilidad política y que asuma en este caso su función que consiste precisamente en asumir

ética política y también en este caso en parte también jurídica para con todos los ciudadanos qué estamos pidiendo

de unos hechos de gravísima gravedad pero qué se está pidiendo en esta moción miren en esta moción se están pidiendo básicamente dos cosas básicamente se piden dos cosas uno se pide al gobierno se pide al gobierno que establezca una comisión una comisión externa independiente no una comisión presidida por un consejero con un viceconsejero

externa independiente que esclarezca los hechos porque insisto es que el sistema de contratación pública de euskadi su credibilidad su imparcialidad está gravemente comprometida por este caso por esta sanción cuáles han sido los argumentos que hasta ahora nos ha dado el gobierno que imagino que los volveremos a oír quizá ampliados

esto no va conmigo dijo el consejero el otro día algo así como no se entiende el motivo de la interpelación a este consejero etcétera

vamos a ver por partes esto de que esto no va conmigo hombre pues por supuesto es que el gobierno tiene la obligación por supuesto es que aparte

pues tiene la competencia en comercio interior tiene la competencia desarrollada de esto en materia de defensa de la competencia anda que no se luchó ante el tribunal constitucional

pues claro que tiene competencia en esto y en este caso es el departamento de economía por cierto al que está adscrita la responsabilidad en materia de comercio interior y en materia sobre todo de

más que el gobierno la administración como tal y por eso todos nosotros todos los ciudadanos somos víctimas somos víctimas por supuesto

pues tiene que tomar cartas en el asunto y exigir y exigir lo que le corresponde y exigir daños exigir responsabilidad a las empresas en segundo lugar

no mire es que esto no ha pasado solo en euskadi ha pasado pues en toda españa hombre

ha estado aquí en euskadi hombre yo el argumento este qué es mal de muchos pues mire no es que hay una situación gravísima que afecta de manera gravísima a nuestra tierra

esos contratos de los que usted me habla resulta que afectan son solamente treinta

oiga pero es que son empresas que contratan habitualmente con la administración es que son contratantes contratistas habituales con la administración de ahí la gravedad qué es lo que le pedimos en consecuencia el gobierno

que además de establecer una investigación que asuma su responsabilidad institucional y que demande a estas empresas

cuáles son los argumentos que esgrime aquí el gobierno y bueno altos cargos relacionados en este caso con la administración pública con este gobierno en primer lugar dice no es que esto era una práctica habitual y asumida es que esto recuerda mucho aquella frase de no es que esto siempre se ha hecho así oiga pues es que esto está mal es una práctica prohibida por las normas de competencia por el sentido común por la ética

hay que perseguirlo este tipo de conductas han que sancionarlas es que si no estamos mandando el mensaje

el segundo argumento que da el gobierno en este sentido no mire es que esto

y resulta que este tipo de contratos pues es que ya no están permitidos entonces ya como ya no están permitidos este tipo de contratos

hombre las empresas siempre adaptan su comportamiento a la realidad

el concertarse para conseguir una contratación pública en un procedimiento aparentemente competitivo

vuelvo a insistir es que son empresas que habitualmente contratan con la administración y siguen contratando con la administración es que siguen contratando con la administración esa es la situación y luego el tercer argumento esto parece el argumento de más de un abogado defensor de las propias empresas pero lo dice el gobierno

esta sanción de la que usted me habla no es firme porque ahora las empresas van a recurrir y tal oiga pero es un tema de las empresas

gobierno vasco el papel de órgano defensor de abogado defensor de las empresas oiga los hechos

los hechos probados están ahí y eso no va a cambiar y aparte el gobierno ya puede activar la maquinaria ya puede empezar a demandar ya puede empezar a demandar ya puede empezar a exigir ya puede empezar a mandar burofaxes

porque es que luego nos vamos ay es que esto había que haberlo recurrido en su momento es que hay que impedir que prescriban los plazos por eso vamos lo que habría que hacer es activar el servicio jurídico

del gobierno vasco y sobre todo analizar también cuál es el coste jurídico de no hacer nada

tiene un coste jurídico también tiene un coste en materia de responsabilidad por qué le pedimos al gobierno vasco que intervenga por qué le pedimos al gobierno vasco que intervenga hombre

y que hay que mandar un mensaje claro hay que mandar un mensaje claro a los mercados al sector económico y a toda la sociedad de que aquí no se van a permitir este tipo de comportamientos

lee usted los correos leemos todos la resolución de la cnmc leemos los correos y no sé a ustedes señorías a mí a veces se ponen los pelos como escarpias se me ponen los pelos de punta viendo

la naturalidad con la que se concertaban estos contratos hombre esto es lo que técnicamente se llama una connivencia no aquí dice el gobierno no hombre señor gordillo

no ha apreciado connivencia no ha apreciado connivencia hombre no podría hacerlo porque los hechos ya estaban prescritos para empezar pero es que si uno se pone a leer si uno se pone a leer el tiempo parece que ya se me está acabando he visto que me ha variado el tiempo pero bueno

ejemplo de un concurso público los pliegos las bases

el quince de mayo la resolución para invitar a las empresas es del siete de junio

es del diez de mayo es del diez de mayo hombre hay más ejemplos tengo aquí los ejemplos los puedo distribuir luego hombre es que esto es connivencia esto es lo que se llama connivencia

no es un pacto expreso pero evidentemente esto es connivencia

está perfectamente asumida por eso aquí

va por su cuenta tal ya los tribunales dirán ya pero aquí hay una responsabilidad política de intervenir por eso la víctima

somos todos nosotros no es un gobierno de un partido político de una coalición determinada es que es toda la sociedad por eso pedimos al gobierno que no se quede de brazos cruzados que intervenga porque le pedimos de verdad

señorías hoy pedimos a esta cámara la confianza para que esta moción salga aprobada muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

buenos días hoy discutimos

un tema absolutamente relevante y de extrema gravedad para todas las instituciones vascas y el conjunto de la ciudadanía un tema que el ejecutivo vasco ha pretendido

enumerando otras comunidades autónomas afectadas como si eso lo hiciera menos grave como pudimos ver el pasado veintiocho de mayo ante las preguntas que formulamos los grupos que hoy firmamos esta transaccional ante esta actitud serán una vez más los grupos a los que les corresponde dar respuesta a unos hechos probados cuya implicación administrativa es firme y que la comisión nacional de los mercados y la competencia ha calificado como infracción muy grave en un expediente sancionador contra varias empresas prestadoras de servicios de consultoría

por un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la administración autonómica

a través de procedimientos negociados sin publicidad o contratos

la legislación nacional trata de asegurar la competencia exigiendo que concurra un número mínimo de ofertas el procedimiento empleado por las firmas consistía en pedir la colaboración de otras firmas para que presentaran ofertas que aseguraban la concesión a la firma que debía ganar el concurso este organismo acredita que estos cárteles manipularon licitaciones públicas durante al menos diez años al comprobarse que la trama se extendía

sin embargo el volumen de hechos que afectan al país vasco es tan alto

y otra red de colaboración norte voy a repetirlo para que quede claro estas consultoras manipularon licitaciones públicas durante al menos diez años

en la que había que apretarse el cinturón mientras un grupo de amigotes con filiaciones políticas muy concretas se han estado repartiendo contratos y fondos

como se denomina eufemísticamente esta práctica eran muy habituales

sobre convocatorias que aún no habían sido publicadas como bien ha explicado el señor gordillo hoy aquí

me voy a parar para presentar también un caso concreto de intercambio de mensajes en uno de los ejemplos de especial gravedad que además así se refiere al mismo

la cnmc que es el caso del puerto de bilbao y cito literalmente

uno de los casos más graves se produce en un intercambio de correos en dos mil dieciséis entre los responsables del puerto de bilbao

referidos a un estudio de impacto del puerto el responsable de compras de la autoridad portuaria

ana andueza datos para configurar el contrato de consultoría

gracias ana voy organizando lo del estudio necesito que me envíes las tres empresas para pedir ofertas es decir

es la que va a sugerir los otros dos ofertantes de cara a que hagan una oferta

quien reciba el proyecto estudio de impacto del puerto auténtica vergüenza y es aquí donde podemos hacernos la pregunta respecto a cómo es posible que en todos estos procesos de licitación durante una larga década

de ninguna mesa de contratación por parte de ningún organismo regulador por parte de ningún interventor por parte de ningún mecanismo de control de la administración pública cómo es posible que no haya habido

que permitiese que esto saliese a la palestra y la administración pudiese establecer los mecanismos de control

una falta de respeto y de capacidad por parte de la autoridad vasca de la competencia del tribunal de cuentas y también de los mecanismos de regulador que tiene la administración pública

respecto a estas administraciones públicas pero la gravedad va más allá de la distorsión que se produce en el mercado que es a lo que se refería fundamentalmente

firmas que podían haber participado en estas licitaciones probablemente por cierto ofreciendo mejores precios o servicios de mayor calidad es difícil

durante este periodo de diez años investigado pero asumiendo que el precio final

auténticamente competitivo fuera al menos un cinco por ciento superior ya estaríamos hablando de decenas de millónes de euros perdidos en este tipo de procedimientos se ha vendido a la ciudadanía durante tiempo

eficaz esta doctrina profundamente neoliberal que desmantela lo público y que afirma que desde lo privado se puede gestionar mejor en este caso en concreto desde luego queda profundamente en entredicho una administración esquelética se ve obligada a subcontratar unos trabajos que más bien competería

pública pero incurriendo en un coste mucho mayor como es este caso es por todo ello por lo que creemos que el parlamento vasco inequívocamente debe demostrar su profunda preocupación por los hechos sancionados

voluntad de esclarecer la posible implicación o implicaciones por eso hemos registrado una batería de iniciativas a este respecto con el fin de escuchar todas las voces

políticas en este asunto y como bien se decía con muchas de estas empresas a día de hoy todavía se sigue contratando no podemos dejar

ha propuesto la prohibición de contratar con varias de las empresas sancionadas entre ellas están firmas con las que habitualmente se sigue contratando es verdad que a día de hoy estamos a la espera del pronunciamiento de la junta consultiva de contratación pública que depende del ministerio de hacienda en relación se tiene o no que prohibir contratar con dichas empresas pero ya a día de hoy la administración vasca de una manera

contratos menores con este tipo de empresas pero no es así recordemos a quién se le planteó la elaboración del primer borrador de proyectos de los fondos europeos el verano pasado que fue precisamente a una de las

están señaladas en esta trama de las consultoras también nos parece razonable

que sea una entidad independiente quien investigue y audite lo ocurrido en relación con esta cuestión y por otro lado y me referiré a ello

son muchos más los contratos que habría que investigar pasados los diez años de periodo de los que se ha constatado que ha habido procesos irregulares de licitación porque si contamos con todos los contratos que

gestando por parte de la administración pública es de imaginar que podríamos

pasados los años que corresponden a este periodo que ha dado de sí estas sanciones por tanto consideramos fundamental que el parlamento vasco se pronuncie en este sentido que haga un pronunciamiento en relación con la gravedad de este asunto de la necesidad de su investigación y

en la comisión formularemos todas las preguntas necesarias para seguir recabando toda la información y también a aquellos responsables que hayan propiciado ya sea de una manera

gracias señora presidenta buenos días de nuevo a todos a estas alturas ya pocos dudan de lo que realmente ha estado sucediendo durante muchos años en el país vasco quien más quien menos sabe del meneo que hay detrás de la contratación pública

negociados amañados tráfico de influencias y por supuesto manejo de información privilegiada una realidad también del país vasco que las administraciones vascas como ha dejado en evidencia la cnmc

su resolución sobre el cartel de las consultoras objeto de esta iniciativa parlamentaria

a ver si ahora que se está tirando un poquito además del hilo un hilo muy interesante conseguimos identificar esas prácticas fraudulentas dónde se producen y quiénes son los responsables nosotros en vox lo tenemos al menos bastante claro duda además dudamos de que el pnv

una tupida tela de araña para hacerse con todo lo que se mueve en nuestra región

de ahí que algunos nombres íntimamente ligados al partido nacionalista vasco en el cartel de las consultoras objeto de esta iniciativa parlamentaria el caso que hoy nos trae aquí es sintomático de algo que lleva mucho tiempo sucediendo en el país vasco como son también las explicaciones que al respecto han dado tanto el lehendakari urkullu como el consejero azpiazu

en cuestión con la administración complicidad entre ellas para hacerse con jugosos contratos públicos con manejo de información privilegiada que solo podía salir de las administraciones vascas y también del propio gobierno vasco

del dinero de todos para beneficiar a unas empresas muy concretas para generar servidumbres todo ello aunque supusiera un sobrecoste considerable para los trabajos a realizar al fin y al cabo el que paga es el pueblo la resolución de la cnmv es muy contundente y en este punto hay que reconocer además el trabajo realizado por el señor gordillo

porque de lo que hemos conocido se puede tirar además y mucho por lo que es posible que más pronto que tarde tengamos datos más precisos de lo que ha sucedido durante muchos años a pesar del freno que el principal partido de gobierno y el propio gobierno van a pisar con fuerza

los malos son las consultoras y no las administraciones vascas hay que ser prudente porque aún se está investigando porque aún cabe la posibilidad de recurrir la resolución este gobierno apuesta de forma decidida por la transparencia y por el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de contratación pública todo ello argumentos de un ejecutivo al que la ciudadanía mira ya con concierta incredulidad sobre el que crece la sombra de la sospecha

sino de que por fin haya quedado en evidencia y pueda además ser probado y aunque digan lo contrario

el epicentro del cartel está en euskadi y es en euskadi donde más contratos públicos están bajo sospecha e investigación

vox va a apoyar el que se investigue todo lo sucedido y que se haga hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga y es que hay mucho en juego nada menos que la confianza de la ciudadanía en las administraciones que gestionan sus dineros

y nuestro futuro y claro que va con ustedes porque todo va con ustedes con el pnv que ha manejado el hilo durante décadas hoy van a cerrar la puerta hacia la verdad

que nada va a impedir que se retraten como lo que realmente son eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak pérez andrea zurea da hitza

señor gordillo señor soto efectivamente ustedes han relatado parte de los hechos concernientes a la investigación que la comisión nacional de los mercados y de la competencia ha finalizado en mayo de dos mil veintiuno con un expediente sancionador

por presentar ofertas ficticias para concurrir de forma concertada a licitaciones pero voy a tratar de completar este análisis y de exponer por qué los socialistas vascos no estamos de acuerdo con la moción que ha presentado su grupo señor gordillo ni con la proposición no de ley del grupo elkarrekin podemos izquierda unida

ha realizado múltiples requerimientos de información a las distintas administraciones licitadoras y ha analizado hasta doscientos contratos públicos y con carácter general la actuación de las diferentes administraciones públicas afectadas en ningún momento ha sido puesta

ni motivación alguna que ampare la apertura de una investigación en torno a unas licitaciones realizadas ya hace años

no se desprende ninguna anomalía en el actuar administrativo en la tramitación de dichas licitaciones

los órganos de control previo oficina de control económico en el gobierno interventores secretarios de ayuntamiento y otras administraciones órganos y mesas de contratación hacen su trabajo emiten los correspondientes informes y validan por consiguiente los procedimientos de contratación

han emitido sus informes a posteriori sobre las cuentas y sobre los contratos de esos ejercicios poniendo de manifiesto todas las salvedades y

mediante prácticas de auditoría generalmente aceptadas por tanto tanto los controles previos como posteriores sirven para verificar que la administración cumple las leyes en este caso además de las de carácter presupuestario las de ley de contratos

velan por el cumplimiento de la ley desde el ámbito público por lo que insinuar que podrían ser las administraciones las inductoras de estas actuaciones contra la competencia

por parte de cientos o miles de funcionarios y profesionales que trabajan en estos órganos de control sabiendo como sabemos que entre los dos cárteles de empresas han resultado perjudicadas una gran variedad de administraciones

es decir supone concluir que todos los funcionarios y gestores que han trabajado y validado estos procedimientos de contratación oficina de control interventores secretarios órganos y mesas de contratación tribunales de cuentas y órganos de control externo han cometido delitos nadie puede negar la existencia de negligencias

pero de ahí a deslizar la idea de que esa trama en multitud de administraciones dispares desde todos los puntos de vista era liderada por las propias administraciones no tiene ningún fundamento además si la cnmc tuviera la más mínima duda con algún dato o prueba

lo hubiera puesto en conocimiento en la justicia ordinaria repito esos órganos de control velan por el cumplimiento de la ley en el ámbito público

en ella se puede observar con claridad que la cnmc no considera responsable a la administración en general de ninguna connivencia con el cártel

en las páginas ciento treinta y cuatro a la ciento ochenta y uno se recogen los fundamentos de derecho y la propuesta de resolución del órgano instructor y acuerdos de la sala y me parece importante destacar dos hechos uno en relación con la ocultación por parte de las empresas y otra por la confianza legítima en el apartado b se tipifican las conductas y dentro de este apartado es importante el punto quinientos existencia de cártel páginas ciento setenta y dos ehun eta hirurogeita hamairu la cnmc dice literal

y al resto de agentes del mercado el hecho de que las empresas crearan cuentas de correo electrónico anónimas para gestionar las coberturas

destinados a la solicitud de coberturas se han hecho con ocultación

se habla de la antijuricidad y de la confianza legítima alegada precisamente por las empresas página ciento setenta y cinco a la ciento ochenta y uno expresando que la participación de la administración les habría generado la confianza suficiente para entender que con su actuación estaba transgrediendo las normas de defensa de la competencia

concluye que no se dan los requisitos de la confianza legítima todo ello con referencias a sentencias del supremo y coliterales como el de la página ciento ochenta que dice tampoco cabe considerar que la administración esté generando indicios externos

excluyen la posibilidad de apreciar un signo externo por parte de la administración que les alentara a interpretar que las prácticas que estaban cometiendo eran lícitas

más extremos que mencionan podrían basarse en negligencia o ignorancia de la administración términos acuñados por la jurisprudencia pero nunca podrían generar la confianza legítima para que las empresas actuaran interpretando

eran lícitas una cosa es detectar errores y otra muy distinta es hacer pensar que la administración haya liderado este asunto por ello las páginas ciento setenta y cuatro y ciento setenta y cinco contienen la conclusión sobre las infracciones

no se menciona ninguna administración por lo que no se atribuye responsabilidad alguna a ninguna de ellas ni siquiera por las posibles negligencias puntuales si las hubiera

izquierda unida muy breve la autoridad vasca de la competencia inicia una investigación preliminar efectivamente y cuando comprobó que el ámbito

de la comunidad autónoma vasca en dos mil diecisiete da traslado de la documentación a la comisión nacional de los mercados y la competencia quien continúa con dicha investigación

titular del expediente administrativo y es evidente que no lo va a hacer por cuánto si lo hubiese considerado así ya lo habría ampliado en su momento el expediente que por cierto el plazo máximo para resolver y notificar

estoy equivocada ya ha terminado pues es de dieciocho meses y en cuanto a que para la realización de la conducta

haya podido existir por parte de las administraciones afectadas un mayor o menor grado de conocimiento o tolerancia es algo que ya se ha analizado e investigado a lo largo del expediente de la cnmc concluyendo con una resolución

doscientos ochenta y nueve en la que se detallan dos infracciones graves constitutivas de cártel se detallan las empresas y los responsables

por lo que insisto no se atribuye ninguna responsabilidad a las mismas por todo ello vamos a votar en contra también de la enmienda transaccional ya que en definitiva recoge de forma más extensa o más ampliada el texto de la pnl original

inguruan jarrerari dagokionez según el nuevo testamento

descansó y en el caso que nos ocupa desde que se conoció la resolución del gobierno vasco el gobierno estuvo seis días desaparecido

habló y cabría pensar que ante un caso de esta envergadura y alcance

el tema pero es que a respuesta de preguntas

y lo que conocemos a través de los medios de comunicación dieciocho de mayo cuando

y claro si uno es como se está presentando aquí víctima de una práctica fraudulenta

son afectadas lo mínimo es interesarse recabar información de los órganos oficiales hacer un análisis y no esa dejación o esa especie de interés

la fecha una resolución que por cierto era accesible al público desde el doce de mayo en cualquier buscador

una infracción única y continuada constitutiva de cárcel

los números doscientos contratos analizados correspondientes al periodo dos mil ocho dos mil dieciocho de los que ciento setenta y tres han resultado ser irregulares

ciento uno corresponden al que ha sido denominado cartel del norte un cartel made in euskadi y por eso respecto a la actitud del gobierno vasco

en el último pleno de control hiciera una especie de intento de igualación poniendo al mismo nivel de afección a todas las comunidades autónomas y sus administraciones enumerándolas de carrerilla algo

dejado deslizar pero lo cierto es los datos son que de ese centenar de contratos fraudulentos de la red norte ochenta y cinco corresponden a administraciones e instituciones vascas sobre todo centrando

contratos analizados por lo tanto doscientos fraude detectado ciento setenta y tres

ochenta y cinco araba bizkaia y gipuzkoa cantabria ocho desconocidos cuatro

gestiona veintiuno consulting son algunas de las empresas de la trama sus directivos

seguramente desde esa bancada muchos de ustedes les conozcan o estén en sus entornos y con esos datos parece lógico por lo tanto

del resto del estado español o que la opinión escrita coincida en situar

además de su actitud en otro intento de minimizar el caso del impacto de las administraciones públicas vascas el no va conmigo el situarse como víctima del caso un lapsus linguae le jugó una mala pasada al consejero azpiazu

y tampoco parece una locura atendiendo a la creciente demanda y externalización de las funciones propias del gobierno hacia estas empresas de consultoría todos estos últimos años

tampoco un dislate vistas las puertas giratorias hacia estas consultoras de miembros y excargos del partido y ahí están

horregatik emango diogu gure babesa y es que la señora pérez ha hecho una especie de cherry picking y nos habla de la página ciento setenta y cuatro y ciento setenta y cinco pero sí lo hemos analizado y lo hemos analizado bien

de algunas administraciones que podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento y podría seguir pero ha hecho usted un cherry picking de libro para justificar lo injustificable

edo gehienak puertas giratorias multidireccionales

y por eso la necesidad de una investigación o auditoría externa porque los órganos de investigación control y fiscalización que pudieran o debieran hacerlo en esta cuestión están totalmente inhabilitados y estoy hablando en el caso que nos ocupa

están inhabilitados están desautorizados y están completamente invalidados

del gobierno vasco porque entre otras cosas no ha detectado nada durante estos años de esta práctica fraudulenta y continuada y han pasado todos esos contratos por sus narices

que durante toda una década estos contratos ni los ha olido

eran invitadas las mismas empresas algo que ha quedado

y las causas pueden ser dos una falta de capacidad de la oficina

o dos tenga que ver que esté dirigida por el señor javier losa del que ya hemos hablado en alguna ocasión y que entre otras cosas fue incluso burukide del araba buru batzar directamente y sea la persona responsable de investigar o de controlar estos contratos

porque es un auténtico despropósito que en otras latitudes estas cuestiones ni se darían no por el despropósito de ser presidido por el señor josé luis bilbao y no me voy a repetir más

ni un atisbo de mala praxis todos estos años no ha sido capaz

los cien contratos que están aquí instalados y está inhabilitada y más la autoridad vasca de la competencia porque es importante señalar que no es la actual

la actual presidenta de la autoridad vasca de la competencia la señora urresola adjudicó un contrato

que está también él personalmente está sancionado

sale bien pero aún es más inquietante es que el doce de mayo cuando salga la resolución la cnmc

se recogiese en la comunicación que por favor esto había sido consecuencia de una denuncia anónima por qué porque esto entre otras cosas da posibilidad a las consultoras de presentar recurso ante la resolución de la cnmc y claro ya empieza a oler un poquito mal

alba urresola nombrada por el propio consejero azpiazu viene del guggenheim donde fue puesta por el señor asier atutxa su persona de confianza en el propio guggenheim socio y responsable actualmente de pvc que está también sancionada o de la señora venturini

la consultora que más sanción ha tenido y que directamente

y terminamos el trío del consejo vasco de la competencia con el señor rafael iturriaga nieva que es el peaje del partido socialista verdad señor arriola

e incluso viceconsejero de seguridad si mal no recuerdo en la época socialista pero la guinda la guinda la pone quien es el director de investigación de cnmc joseba andoni bikandi anton bikandi

estos son los órganos los órganos de fiscalización control y auditoría esto es esto es lo que hay en este país

de la avc que luces está completamente inhabilitada para cualquier actuación que tenga que ver con el caso de las consultoras del cartel del norte

porque todo está por pasar donde casi nunca pasa nada eskerrik asko estarrona jauna

realidad o ficción es el título de la película de hoy

hoy también se ha especulado y se ha hecho demagogia el tono empleado por ustedes

de hecho así se titula la iniciativa presentada por elkarrekin podemos ustedes hoy se deslizan hacia las irregularidades de la administración y eso es una falacia y como partidos políticos de este parlamento no deberían ser tan irresponsables especulando con mentiras y haciendo sus propias suposiciones e hipótesis que están muy lejos de la realidad

resuelve que en las licitaciones de los departamentos del gobierno vasco no se ha acreditado indicio alguno de connivencia ni han ofrecido confianza legítima a las reclamadas ya lo ha justificado

en citarlas beraz no se ha acreditado indicio alguno de convi connivencia ni convivencia ninguno

un desenfoque absoluto hacen una utilización espuria del parlamento vasco mezclan contrataciones irregulares con prácticas anticompetitivas puro

todas las licitaciones promovidas por el gobierno vasco fueron en su momento fiscalizadas por los órganos de control interventor y por el tribunal vasco de cuentas públicas

organismos independientes señor estarrona lotsa eajren ingurukoak esandakoak

nor datorren estarrona jauna ustedes bien saben

pero la competencia o la responsabilidad de vigilar el correcto cumplimiento de las normas reguladoras de la competencia está residenciada en otros entes

la autoridad vasca de la competencia lo analizará y actuará ya se hizo con el inicio de este expediente y se hará ante cualquier indicio de sobrecostes en la contratación sobrecostes en lo que nos ocupa que la señora gorrotxategi ya nos adelantó en la rueda de prensa y hoy también el señor soto algo que ni siquiera pudo cuantificar

pero sí lo hace el grupo elkarrekin podemos

y las apoyamos en su labor pero no todos aquí pueden decir lo mismo eh bildu por ejemplo a eh bildu no le gustan estos organismos es más pide su supresión pero claro como esta resolución le es útil para su estrategia en contra del gobierno callan y arriman el ascua a su sardina

el tribunal vasco de cuentas la labor realizada por el tribunal vasco de cuentas está contenida en los informes de fiscalización de la administración general de la cav de las diputaciones forales

y se remiten todos ellos al parlamento vasco informes sobre los que ningún grupo político ha hecho comentario alguno no ha solicitado ninguna explicación ni siquiera ha tratado de modificar el plan de trabajo del tribunal vasco de cuentas públicas resumiendo

y por el tribunal vasco de cuentas públicas pero las presuntas actuaciones ilegales que algunas personas físicas o jurídicas del sector privado pudieran haber llevado a cabo quedan en todo caso fuera del ámbito legal de actuación del tribunal vasco de cuentas ya que son funciones de las autoridades de la competencia nuevamente confunden los planos

insta en su iniciativa al gobierno vasco a realizar una investigación sobre los contratos negociados cuando uno

y dos este trabajo y fiscalización ya lo hace el tribunal vasco de cuentas públicas así que la única vía adicional para resolver cualquier conflicto de este tipo son los tribunales ordinarios

y cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la audiencia nacional por parte de las empresas citadas por tanto

debemos mantener una actitud de prudencia para no señalar culpables cuando el procedimiento

no hay título jurídico bastante para iniciar una demanda no hay

una base que sí podría haber por todas las acusaciones de hoy para acudir a los tribunales

lo hoy difundido aquí es de juzgado de guardia pero para su desgracia son acusaciones injustificadas tal y como se demuestra en la resolución de la cnmc o en la sentencia del tsj del país vasco hoy citada

que no es de los reclamantes indica que las actuaciones anticompetitivas eran ignotas para las administraciones contratantes no vamos a permitir que vinculen suciamente al partido nacionalista vasco con estas operaciones anticompetitivas entre empresas privadas ya lo hizo

y hoy lo han vuelto a hacer varios grupos políticos porque en esta resolución no se sanciona ni de lejos ni al partido nacionalista vasco ni al gobierno vasco se sanciona a unas empresas

muchos de ustedes estarían también manchados eh bildu por ejemplo en el hecho probado treinta y cuatro año dos mil doce gobierno municipal en manos de la coalición abertzale partido popular en los hechos probados treinta y siete en galicia tres en murcia nueve en madrid

todos gobernadas por el pp significa eso que hubo connivencia

y hay un dato que me ha parecido interesante y que lo puso sobre la mesa hace unos días el diputado general de álava ramiro gonzález en todas las legislaturas analizadas en la diputación foral de álava desde dos mil siete hasta dos mil veintiuno

ahora investigadas pero saben qué ejecutivo fue el que más contratos adjudicó a estas empresas pues fue precisamente un gobierno del partido popular acaso nos han oído a nosotros pedirles responsabilidades a su partido

acaso nos han oído hablar de dramas corruptelas y demás joyas no y no lo vamos a hacer aunque ustedes sigan por este camino de falsedades y graves acusaciones

las administraciones afectadas fueron consideradas como víctimas de los comportamientos ilegales de las empresas pero ustedes son más de culpabilizar y sobre todo si es al partido nacionalista vasco si ustedes creen que van a obtener réditos políticos embarrando todo asunto

nos vamos habituando en sus tácticas de uso interesado ejemplo reciente la pandemia más del pasado los comedores escolares también hoy mencionados por el señor gordillo

uno no hubo connivencia el tsj del país vasco condenó a las empresas no al gobierno vasco dos

tres el gobierno vasco modificó las licitaciones para imposibilitar la colusión y cuatro en la comisión de investigación por este asunto el partido popular

desautorizó a su parlamentaria la señora bengoechea rompiendo lo acordado con nosotros

porque primó la utilización malintencionada de este asunto frente a la visión de construcción y mejora del sistema

decía también el portavoz de elkarrekin podemos que esto no es más que la punta del iceberg y que esto solo es una parte del problema porque son contratos concertados a dedo eso es lo que quieren ustedes pero

euskadi es la segunda comunidad que menos utiliza la vía de contratos menores

el setenta y tres por ciento de contratación vía procedimiento abierto por lo que es destacable la transparencia la publicidad y la concurrencia que se emplea en la metodología de contratación del gobierno vasco lejos de sus acusaciones de uso indiscriminado de los contratos menores

no podía faltar la gran fase de elkarrekin podemos

ustedes creen que el conocimiento prestado en los servicios contratados puede obrar en manos de la administración

imposibilita que la administración cuente con todo el conocimiento no lo hacen ustedes podemos en los ministerios del estado cómo hará por ejemplo la administración en una materia tan especial como la ley de protección de animales

pero por qué porque el objetivo como decía es realizar el mejor trabajo posible con el mayor conocimiento del que no dispone la administración porque es imposible dicen ustedes también que el mito del buen gestor del partido nacionalista vasco se está resquebrajando

por el partido popular y podemos cada vez que les oigo lo de

están reconociendo que toda la vida han creído en la buena gestión del partido nacionalista vasco más que nadie

porque toda la vida no han tenido otro objetivo que resquebrajar al pnv y de qué manera desde luego

pero este grupo seguirá a lo suyo trabajando por una administración diligente y transparente que cuente con los debidos mecanismos de control en la contratación y eso no es quedarse

muchas gracias señora presidenta mire la señora berrojalbiz yo creo que de manera amistosa me suele acusar de pitoniso o de pitonisa algunas veces y claro aquí la pena es que al final voy a acabar teniendo razón en la previsión que he hecho yo he intentado

al fondo de la cuestión pero voy a intentar sintetizar y desarrollar algún punto

lo que destaca de las intervenciones con todo el respeto de las intervenciones de los grupos que apoyan al gobierno es que parece que están más preocupados por ejercer de abogados de las empresas que por ejercer

es que yo veo los argumentos de la señora pérez

en el curso de su investigación y es que vuelvo a insistir es que estaba prescrito porque la prescripción de la responsabilidad de las administraciones en este punto en españa es abrumadoramente bajo no en otros es una cosa que se dice bastante en europa sube un poquito ha subido ya hasta cinco años el tema de la prescripción

de recuperación pero todavía esto está pendiente lo de los informes de auditoría una vez más yo creo que

yo creo que se solapan o se confunden cosas una cosa es el procedimiento de adjudicación de un contrato y otra cosa es la auditoría que luego se hace es decir una auditoría evidentemente va a salir puede salir perfectamente bien de un contrato que se ha adjudicado de mala manera

por cierto que cuando los órganos de control a lo mejor han hecho sus auditorías es probable que no hayan tenido delante esta resolución de la

es otro tema el tema es cómo ha sido el procedimiento de adjudicación

palabras textuales negligencias o errores puntuales pues mire sea por connivencia sea por negligencia sea

la resolución la propuesta de moción está redactada además en un lenguaje que intenta acotar bastante y se refiere como lo ha dicho la señora berrojalbiz solamente a los que han sido durante una época los procedimientos negociados

como ha dicho a diferencia de lo que ha dicho la señora pérez no es

muy específica y muy significativa ha hecho mucho hincapié es interesante en el caso de la confianza legítima claro es que estamos es una cuestión muy interesante esta

por una parte claro prescribe el tema prescribe el plazo por cierto en el tema de prescripción que ha comentado otro argumento muy interesante para la defensa de las empresas

está también establecido ahí pero bueno insisto es que da argumentos muy buenos para la defensa de las partes decía que el tema de la confianza legítima es un aspecto que claro si encima hay confianza legítima es que al final se van todos de rositas si encima hay confianza legítima va a pasar digo otra vez citando un caso muy interesante que nos ha recordado la señora berrojalbiz el caso de comedores escolares que es que encima se les bajó la multa a las empresas porque

había creado una situación asimilable a lo que es la confianza legítima oiga es que entonces

hay un perjuicio clarísimo para el contribuyente para el ciudadano

a una cuestión muy determinada y además en la que luego el gobierno vasco asuma un papel

se ha recordado también lo ha hecho el señor estarrona me parece recordando alguna frase muy interesante que también la cnmc de la competencia

no voy a entrar ahí pero simplemente digo la manera yo qué sé tan contundente en la que se oponen a una investigación me parece muy negativa y sobre todo es que lo único que va a hacer es

aquí hoy cuentan con los votos necesarios para tumbar esta iniciativa

es decir van a vencer evidentemente van a ganar la votación es mera aritmética

es que no han convencido tampoco a la sociedad muchas gracias señora presidenta eskerrik asko gordillo jauna elkarrekin podemos ezker anitza soto jauna zurea da hitza

hombre la señora pérez nos ha leído algunos de los apartados del informe

respecto a la cuestión de la falta de responsabilidad por parte de las administraciones de cara a esa defensa que hacían las empresas

la confianza generada o la confianza suficiente

presentando sus proyectos o la licitación en la que estaban presentándose pues no en fin no incurría en ningún tipo de ilegalidad y es cierto que la

exime de responsabilidad a las empresas en su informe pero eso no resta que haga referencias del tipo y leo textualmente del contenido y tono de las comunicaciones

puede inferirse un clima de colaboración o consentimiento estructural así como la certidumbre y confort en cuanto al funcionamiento en la práctica es decir que

que existían indicios de un consentimiento estructural en la práctica de adelantar información en procesos de licitación del mismo modo que

se dice textualmente en la resolución y también se ha dicho aquí por parte del señor estarrona que algunos hechos de agentes de la administración podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento y lo dice textualmente y también en ese mismo artículo se referencia y así lo hizo la

emitida están estudiando si derivarla a la fiscalía entonces sí que creemos que hay evidentes indicios para investigar esta cuestión y además es que cuando afirmaba que esto puede ser la punta

de un entramado mucho más amplio básicamente a lo que me refería era a que a partir de lo que se ha estudiado si tiramos hacia adelante si analizamos

con doce de las consultas vinculadas al cártel norte

ciento ochenta y nueve millónes en el sesenta por ciento de cuatrocientos cincuenta y nueve contratos analizados solo existe una empresa que se haya presentado al proceso de licitación una cifra similar veinticinco son contratos menores para nosotros y para nosotras la interpretación de los artículos ciento veintidós y ciento sesenta y dos

contratos en los que solo ha habido un ofertante en el proceso de contratación debiesen ser

consecuentemente posteriores debiese también de hacerse un análisis y creemos que obviar que la autoridad vasca de la competencia de euskadi ha perdido toda credibilidad

y que la externalización del gobierno ha sido una práctica habitual y esto ligarlo a cuestiones de procesos negociados en

de lo que se ha planteado subcontratar o externalizar por parte del gobierno vasco encontraremos ejemplos de una cuestión puramente técnica en la que se necesita un asesoramiento técnico

que entendemos que debiesen de partir de una iniciativa por parte del gobierno vasco no en ningún caso de consultoras

que la primera propuesta de proyectos estratégicos para los fondos europeos fuese determinada por una consultora

en coordinación con el gobierno vasco pero en fin tuvo una participación evidente

vamos y además que une ambas orillas

una de las consultoras precisamente que está en entredicho a razón de la cuestión de las licitaciones ilegales entonces

si eso no es externalizar cuestiones que son esenciales de la administración pública ya me dirán ustedes no estamos hablando en fin de la gigafactoría de baterías eléctricas

como tratamos hace unas semanas y que sí es una cuestión bastante técnica estamos hablando de cuestiones estratégicas de calado para las administraciones públicas

lo que se está afirmando es que hace falta por parte de la administración mayor investigación o

poco se ha hecho por parte del gobierno vasco en relación con esta materia que se inicie un proceso de investigación y si hay fallas

de licitación que se corrijan y si los órganos de control

no vemos ahí dónde hay un problema para los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno no estamos aquí haciendo una no estamos señalando

en ningún caso ni estamos haciendo reproches generales sino que consideramos que si ha habido problemas estructurales en el proceso de licitación estos debiesen ser corregidos

gracias presidenta es imprescindible

con las buenas prácticas en la contratación pública y con la aplicación estricta de la legalidad vigente y claro que se debe mantener una actitud de prudencia especialmente porque el procedimiento sigue abierto ahora cabe un recurso contencioso administrativo en la audiencia nacional

que sea requerida es más el gobierno está poniendo a disposición del parlamento toda la información solicitada en relación con las contrataciones que se han llevado a cabo

y la mejor forma de evitar que se produzcan estas prácticas restrictivas de la competencia en la contratación pública es reforzar la transparencia y mejorar la regulación normativa

faceta administrativa como ha sido por ejemplo la supresión de los contratos negociados sin publicidad por razón de cuantía efectivamente

y por suerte ha creado otro nuevo procedimiento de adjudicación que debe extenderse aún más y se debe trabajar que es el procedimiento abierto simplificado está concebido precisamente para eso

y para que su duración sea muy breve y la tramitación muy sencilla pero ojo sin descuidar la necesaria publicidad y transparencia en el procedimiento de licitación del contrato al mismo tiempo es fundamental que las administraciones públicas velen por la correcta aplicación de la legislación de la contratación pública y de modo especial por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia

de estas buenas prácticas incluso con manuales de buenas prácticas estas son las principales herramientas que pueden permitir una mejora en la contratación y no

unas investigaciones que parece que son reclamadas simplemente con el ánimo de corresponsabilizar a las administraciones públicas en general y al gobierno vasco en particular de unas conductas

de unas determinadas empresas licitadoras por todo ello no hemos entendido ni el fondo ni los tiempos que justifiquen esta

el gobierno vasco lejos de ser parte de dicho expediente habría de ser considerado como se ha dicho aquí como una de las víctimas del supuesto cartel y de las supuestas prácticas restrictivas de la competencia el parlamento a través de nuestras iniciativas realizamos una actividad de impulso

pero pienso humildemente que no procede instarle a recordarle unas actuaciones que están dentro de su competencia y que las analizará en su caso y en su momento por otra parte presentan esta moción cuando han solicitado información documentada en relación a las contrataciones del gobierno vasco con las empresas de consultoría

y esta información todavía no se ha facilitado entre otras cosas porque no ha concluido el plazo de la remisión

sinceramente responden a otros intereses más que demostrar un interés real por dicha investigación y por cuáles pueden ser las mejoras a introducir para evitar a futuro este tipo de actuaciones y por último en cuanto a

comentarle que cuando habla no le veía que cuando habla de que los órganos de control están inhabilitados

y además sí que indirectamente o aunque no se quiera se está cuestionando a muchísimos funcionarios y profesionales que sí trabajan en estos dichos órganos de control
simplemente quería dejar eso muchas gracias eskerrik asko

dira hechos datos y extractos del informe y todos constatables por lo tanto eso sí que no le permito que cuestione la responsabilidad de euskal herria bildu en esta materia

que no son las administraciones públicas las investigadas sino las empresas indicios y pruebas y acertaba porque han sido estas las investigadas

hay que investigarlo hay que investigarlo hay que depurar responsabilidades porque puede que no haya habido y entonces será bueno para toda la sociedad vasca y si ha habido habrá que depurar responsabilidad y también será bueno y es que he

de que podría no tener amparo en nuestro ordenamiento que lo han repetido también otros portavoces de la cámara pero

en el propio tribunal superior de justicia del país vasco son las empresas es la propia apelante en su jurisprudencia en su sentencia

habría podido observar cómo eran las propias entidades públicas licitantes las que solicitaban a la futura empresa adjudicataria el nombre de dos empresas a invitar para cumplir con las condiciones que impone la ley

no son prejuicios no son hipótesis hechas por euskal herria bildu no lo son

que ha acreditado que lo que ha hecho el gobierno vasco en esta primera fase

está muy bien que todas las licitaciones promovidas por el gobierno vasco fueron en su momento fiscalizadas por los órganos de control interventor y por el propio

completamente agotado completamente agotado y lo está independientemente de los funcionarios porque los consejos y ya sabemos cómo se nombran y ya he dicho antes

y la alineación de estos consejos y de la oficina de control económico del tribunal vasco de cuentas públicas así

esto no hace más que certificar que ese modelo de los órganos de control auditorías fiscalización de las administraciones públicas vascas está completamente

está inhabilitado y lo repito y lo está en utilidad pero sobre todo lo está en credibilidad

por ejemplo en la memoria de la fiscalía todos los años constatado y así lo dice el fiscal de delitos económicos

a favor de las buenas prácticas y contra las corruptelas y el clientelismo tan arraigado en estas latitudes porque esto que hoy estamos aquí debatiendo es una práctica muy arraigada y lo dice incluso la propia presidenta alba urresola

en euskadi que las redes clientelares en este país están muy instaladas

y ante esto balones fuera habló de otras comunidades cuántos casos hay usted hizo un contrato en dos mil doce oh con una consultora

frente a ochenta y cuatro izan ere nik uste dut

eskerrik asko legebiltzarburu andrea realidad o ficción lo decía antes

no soy invisible pero a veces también me lo imagino pienso y fantaseo

podemos transformar cualquier realidad con el anhelo o no de que se cumpla podemos mentir

podemos decir alguna media verdad o mentiras creíbles pero al final la realidad se impone

es la que es esta experiencia personal la de soñar o imaginar que esta pandemia no nos ha sacudido por ejemplo la podemos llevar al terreno de la política a debates como el de hoy

pero poco de realidad y lo cierto es que hacer política desde las falsedades o de las tergiversaciones es mucho más fácil y mejor para los objetivos que persiguen que comprometerse a arrimar el hombro y cooperar para entre todos hacer que cada día la administración sea más transparente y tengan mejores prácticas pero ustedes son más de presunción de culpabilidad que presunción de inocencia

ya tenemos su sentencia para qué queremos entonces una investigación no resulta muy edificante y la sociedad estoy segura de que así

que quienes no tienen ninguna responsabilidad de gobierno se dediquen a emplear la mentira como estrategia política con el único objetivo de ensuciar la imagen de quién como este gobierno

para que este país progrese y sea un ejemplo de buen hacer en la administración con errores por supuesto pero sin falacias interesadas

se les facilitará la información requerida por parte del gobierno vasco y se les ha explicado su proceder pero ustedes a lo suyo menos mal que vivimos en una sociedad

de la realidad se han presentado hoy aquí con toda una batería de afirmaciones que con los hechos en la mano

nos hablan y no en hipotético de que hay connivencia entre algunas empresas sancionadas y la administración

que el gobierno vasco se ha convertido en la mejor defensa de las consultoras es que no dicen ni una sola verdad es que nada de lo que dicen tiene algo que ver con la práctica cotidiana

así que sus fantasías se alejan y mucho de la realidad

cómo no del pnv que alientan malas prácticas fantasean con investigaciones al gobierno vasco pero de repente el cántaro se cae

de una institución limpia transparente rigurosa y con propósito de mejora

juegan a juegos de artificio con acusaciones muy graves que les salen gratis porque mentir es más fácil que reconocer que en euskadi sus instituciones están comprometidas con la rigurosidad y las buenas prácticas y no se olviden de una cosa cuando acusan al gobierno

máximos responsables lo ponen también en los funcionarios cuyo trabajo es fundamental para detectar estas consultas cuestionan su proceder y sus tareas de control

de la dificultad para identificar y probar la existencia de este tipo de conductas

y el plazo de tiempo tan amplio necesitado para resolver y ahí la razón de ser de las autoridades de la competencia constituirse en organismos especializados y con capacidad fiscalizadora y sancionadora

por lo tanto las administraciones ni pueden atribuirse esta competencia ni disponen de las facultades lo que sí corresponde a las administraciones es la responsabilidad del cumplimiento de la normativa en materia de contratación que promuevan el seguimiento de las buenas prácticas con el fin de detectar irregularidades

que no se hace cuando se promueven este tipo de actividades y de buenas prácticas

control y formación en buenas prácticas está centrado el gobierno porque son

una mejora en la contratación pública acaso creen que una investigación

no solo puede ayudar a un propósito al suyo

de unas conductas ajenas a ellas porque aunque les incomode

el índice europeo de calidad de gobierno donde el gobierno vasco es el mejor del estado y el décimo mejor de europa en calidad institucional imparcialidad en la prestación de los servicios públicos y en nivel de corrupción en el último índice disponible de transparencia de las comunidades autónomas

y por la parte que nos corresponde a los partidos políticos el sociómetro del mes pasado

en la resolución de los problemas que tenemos la política no se hace en base a encuestas

y eso es precisamente lo que esta encuesta nos enseña y a lo que nos anima

de estar absolutamente en contra de todo es o no acertada pueden persistir o rectificar nosotros siempre estaremos comprometidos

beranduegi dela neurriak hartzeko edo behintzat askatu ditugun indarrak kontrolatzeko he dicho que el coche ha provocado por ejemplo

y puedo dar datos sobre esto y sobre otras cuestiones a las que me he referido en la introducción

el automóvil provoca uno coma tres millónes de muertes en accidentes de tráfico cada año

cincuenta y uno fallecimientos al año en la comunidad autónoma vasca

que en el ámbito de los accidentes un coche eléctrico no superaría al cien por ciento la asistencia de accidentes pero sí se inserta de dos maneras en un paradigma de movilidad que ayudará a reducir esos accidentes por un lado la introducción de nuevas tecnologías y ayudas a la conducción

tecnológico en el cual la velocidad y la potencia van a perder su centralidad en detrimento de otras cuestiones como la facilidad de uso la conectividad o la propia seguridad

es que el coche ha provocado el automóvil privado ha provocado decenas de millónes de víctimas en el último siglo ha provocado esas víctimas en accidentes y también las ha provocado a raíz de la contaminación decía el otro día en otra intervención que de las emisiones de ce o dos sobre el cambio climático parece ser que ha dejado en segundo plano salvo en algunas ciudades con problemáticas de contaminación muy agudas la otra dimensión contaminante del automóvil

a la salud que eso provocan directamente las muertes hay diferentes estudios en el estado español

por enfermedades provocadas por las emisiones de los automóviles y aquí sí que hay un factor diferencial que los coches eléctricos no van a hacer y los coches térmicos están haciendo

datos similares para francia en barcelona solo en la ciudad hablan de mil fallecimientos

por el automóvil y no tengo un estudio concreto pero por una regla de tres de la aplicación de la comunidad autónoma vasca en función de su población

eso determinaría que más de cuatrocientos personas fallecen cada año en la comunidad autónoma vasca por la contaminación automovilística

ese coste en vidas humanas pero también se ha calculado el coste económico que generan los automóviles con motores a combustión y las furgonetas con el mismo sistema

costes externos por contaminación del aire que determina que coches y furgonetas eléctricas mediante su contribución las enfermedades y por tanto el coste económico que genera el tratar esas enfermedades y su contribución al cambio climático generan anualmente un coste de trescientos cincuenta millónes

en estas realidades que afectan como decía a la salud y al cambio climático tenemos además hablando de costes una balanza comercial en la cual el déficit energético la necesidad de importar productos energéticos fundamentalmente petróleo y gas para alimentar esta sociedad cochecéntrica nos genera un déficit en este apartado de tres mil millónes de euros anuales es verdad que se compensa

relacionadas con el mundo del motor pero ese déficit energético ese centralidad de los combustibles fósiles nos lleva a ser deficitarios por la cantidad

por tanto y para terminar esta presentación a modo de resumen en la comunidad autónoma vasca cincuenta y uno personas fallecieron por accidentes de tráfico el año dos mil diecinueve la media vamos a tomar cincuenta

mueren anualmente por accidentes y por enfermedades producidas por el coche trescientos cincuenta millónes nos cuesta las externalidades

millónes de euros nos sale la factura energética eta hori guztia batere

casi de chiste saber si desde un punto de vista termodinámico son los seres humanos o los gatos los que utilizan de forma más eficiente un automóvil pues bueno supongo que imaginaríais que hay gato encerrado en la pregunta evidentemente hay gato encerrado la respuesta es que es el gato

porque un coche fundamentalmente un coche de motor térmico es una máquina de hacer calor

los gatos utilizan eficientemente forma termodinámica un coche porque lo utilizan para su función principal el setenta por ciento

en calor solo el treinta por ciento va a la función para la que teóricamente están diseñadas esas máquinas que es el movimiento por no hablar de otra serie de ineficiencias en todo el proceso

porque cuando se hacen cálculos de lo que contamina el coche eléctrico y el coche

que sale de árboles que están al lado de las gasolineras pero no hay un coste hay un coste que supone una pérdida de energía en todo el proceso desde la extracción y el bombeo del petróleo su transporte su refinado transportarlo nuevamente eso provoca además catástrofes medioambientales provoca guerras provoca conflictos geopolíticos etcétera etcétera y todo este sistema tan

en términos medioambientales en términos de salud tan ineficiente en términos energéticos tan caro en costes económicos

por dos razones fundamentales primero por la increíble densidad energética

de la inagotabilidad de esta fuente de energía la densidad energética se mantiene a pesar de la ineficiencia pero la agotabilidad es evidente que está constatada y además

sobre el cambio climático del uso de este tipo de combustibles pero hay una buena noticia no es para echar las campanas al vuelo pero las cosas pueden cambiar eta aldaketak aldaketak gertatzen dira

hamarkada bakar batean en el año dos mil diez

sumando el resto de coches electrificados se llega hasta un ochenta y tres por ciento para completar un treinta y uno por ciento del parque automovilístico a día de hoy compuesto por coches eléctricos

tiene fuentes renovables de energía en abundancia y tiene además incluso paradójicamente

todo este tipo de apuestas pero cuando noruega hizo esta transición entre el año dos mil diez

nosotros en estos momentos que no tenemos el dinero del petróleo ni el nivel de renta ni el acceso a las energías renovables que tienen noruega pero a día de hoy

de la irreversibilidad de su implantación nos da muchas mayores ventajas que las que tenía noruega en el año dos mil diez sabemos que la tecnología es viable sabemos que los cambios tecnológicos y las mejoras productivas están haciendo que el producto se abarate y sea cada vez más accesible y sabemos que es la opción

de esta década nuestra propia transición similar o incluso superior a la que ha hecho noruega porque la práctica a pesar de las ventajas del coche

y ya lo hemos explicado en otras ocasiones pero creo que al hilo de la argumentación es importante señalar nos estamos quedando atrás el estado español está retrasado con respecto a europa

tanto en infraestructuras de recarga como en número de vehículos electrificados sobre el total

por debajo de la media por tanto es imprescindible que se realice esta transición pero es imprescindible también para que se realice que se le dé un fuerte impulso político un impulso político que a día de hoy no se ha dado y que a día de hoy venimos a reclamar eta egia da gaur akordio bat egin dugu akordio bat gobernua sostengatzen duten

falta den bultzada horren lehenengo ariketa behintzat egin ahal izateko no podemos olvidar y no queremos pasar por alto el hecho de que el coche eléctrico también contamina contamina en su producción contamina en su carga si el mix energético que le alimenta a pesar de ser eléctrico tiene emisiones a la hora de generar esa electricidad

de pequeñas partículas de los frenos de las ruedas ocupa espacio también puede provocar accidentes y es ineficiente

individual por tanto no estamos hablando de la panacea en sí mismo lo que sí estamos hablando es de un nuevo modelo de movilidad en un cambio de paradigma dentro del cual la movilidad reservada al coche particular quede exclusivamente ligada al coche eléctrico porque es verdad que a pesar de sus desventajas objetivas

con los coches normales el nivel de emisiones es cero en cuanto a gases contaminantes y en cuanto a gases de efecto invernadero incluso con el peor mix energético de la unión europea es un treinta por ciento menor en emisiones de ce o dos es un sesenta por ciento menor

de producción energética de la unión europea es decir produce un tercio de las emisiones y además con unas perspectivas de rápida evolución para que vaya produciendo

la transición a una nueva movilidad no pasa exclusivamente por el despliegue del coche eléctrico pero sí pasa porque todo el uso de coche particular sea con coche

y parece que inevitable así que nos parece muy bien nos parece adecuado nos parece oportuno que en este parlamento dediquemos un poco de tiempo a pensar y a planificar en la medida de lo posible esta realidad que va a ser enseguida

van a ser muchos los cambios que vamos a vivir en los próximos años en cuanto a movilidad la sustitución de los

los vehículos autónomos va a ser otro los vehículos compartidos

que se van a producir en este ámbito y todos ellos están relacionados entre sí de forma que estamos cerca de un auténtico cambio de paradigma en este tema que afectará a nuestros hábitos de vida pero también afectará a nuestro medio ambiente a nuestra industria y a nuestra economía respecto al cambio

la que alimentará a los coches pequeños de la que seguramente alimentará a los vehículos industriales porque no tiene por qué ser la misma pero sí parece

y esto va a exigir un esfuerzo importante por establecer una red de recarga en nuestras casas calles y carreteras

ya pusimos de manifiesto una cuestión importante y es que todavía no se sabe qué tipo de baterías son las que finalmente van a impulsar a nuestros coches eléctricos en el futuro

porque son caras pesadas y lentas lentas en la carga y sabemos también que en todo el mundo se están desarrollando nuevas tecnologías de electrolito sólido

pero todavía no está claro cuál será la tecnología que finalmente se hará con el mercado a partir de aquí poco sabemos

porque se trata en realidad de un cambio global acelerado con diferentes niveles de afectación

y que dado nuestro pequeño tamaño no vamos a poder controlar en absoluto lo que nos va a obligar a estar muy atentos para ver por dónde evolucionan las tendencias

lo más rápidamente posible a ellas y cómo estamos hoy en euskadi en este tema pues lamentamos tener que poner de manifiesto

nos estamos quedando descolgados es cierto que en los últimos años se han hecho algunos esfuerzos por electrificar la movilidad en euskadi pero es evidente

realizando en otras comunidades autónomas y menores

con toda claridad este gráfico pero vayamos por partes en mayo del dos mil diecinueve el informe de electromovilidad de anfac

país vasco cataluña y madrid se posicionan como las comunidades autónomas líderes en electromovilidad esto hace dos años dos años después

la décima y a estar por debajo de la media en solo dos años hemos pasado de estar en las punteras

que euskadi está peor que otras comunidades autónomas respecto a infraestructuras y respecto a mercado y en realidad una es consecuencia de la otra ya que si el usuario no se siente cómodo o tiene dudas de cómo va a poder cargar su vehículo

solo el tres por ciento el tres coma ocho de las infraestructuras de recarga de españa están en euskadi

lo que hace que la recarga sea excesivamente lenta con potencias menores de veintidós el tiempo de carga completa de un vehículo eléctrico puede llegar a ser hasta de diecinueve horas

ese tiempo de espera para tener la carga completa es demasiado larga y a fecha de hoy en todo el territorio solo tenemos diez puntos de recarga de acceso público con una potencia

que aseguren la carga la recarga completa en menos de quince minutos es decir necesitamos invertir más en infraestructura de recarga porque no lo estamos haciendo con la misma proporción

podemos decir que el tren de la electromovilidad todavía no ha salido de la estación es cierto

es cierto pero por todas partes están sonando ya las alarmas que anuncian que las puertas se cierran y nosotros vamos tarde

la diferencia crece y euskadi se queda atrás en esa carrera hay países de nuestro entorno como pueden ser francia alemania o incluso portugal que nos llevan más de dos años de adelanto

son equivalentes a las que tenían ellos en dos mil diecinueve y esta circunstancia que ya de por sí es un problema no es lo peor

y vemos que hace un año estábamos a once coma siete puntos de la media europea en el índice de electromovilidad de anfac ahora estamos a veintitrés coma seis puntos

que lo estamos haciendo el asunto nuclear es que crecemos

la distancia se acrecienta en vez de reducirse es cierto que tenemos diferentes iniciativas que pueden favorecer la electromovilidad

el plan renove el plan de ayudas en transporte y movilidad eficiente dotado con dos millónes de euros pero necesitamos articular todas esas iniciativas con un plan porque todas estas ayudas intentan remar a favor de la electromovilidad pero tengo mis dudas de si son suficientes y sobre todo si todas

por ello consideramos necesario actualizar el plan integral de movilidad eléctrica que publicó el eve en el año dos mil dieciocho con una visión dos mil treinta este plan debe tener en cuenta la rápida implementación del coche eléctrico que estábamos teniendo en otros tiempos

debemos tener unos ejes de actuación unas iniciativas concretas y un presupuesto proporcionado la idea es alinear todos los esfuerzos para dejar de estar en la cola en lo que se refiere a este tema además tenemos que evaluar las iniciativas recogidas en el plan correspondiente

a estar como estamos por debajo de la media tenemos que entender qué es lo que hemos hecho mal qué es lo que ha fallado qué es lo que no ha funcionado como debería y debemos de corregirlo con rapidez queremos nos gustaría que este plan se trajese a parlamento y que lo pudiesemos debatir porque

en este tema que nos parece vital que va a afectar a esta generación y a las siguientes

pero dicho todo esto tenemos que decir que la propuesta que trae hoy aquí bildu

ni que esté bien enfocada ni que sea lo que euskadi necesita en su primer punto propone reducir las necesidades de movilidad de las personas y sustituirlas por un transporte público y compartido

ir a donde quieran cuando quieran y como quieran y que el papel de las instituciones no es imponerles transportes públicos o compartidos sino ofrecerles alternativas para que ellos elijan

si son un medio de transporte eficiente que la ciudadanía decide comprar y usar

los ciudadanos tienen que poder ir a madrid en tren en coche en avión en autobús o en bicicleta pero sobre todo que sean ellos mismos los que decidan cómo van

en su segundo punto la propuesta plantea la creación de una comisión intergubernamental

no puedo por menos de acordarme de aquella famosa frase que se le atribuye a napoleón

y si quieres que algo se demore eternamente nombra una comisión en el tercer punto

vendidos el objetivo parece nos parece demasiado ambicioso y poco realista

sobre este tema dice el objetivo ha de ser situar la edad media del parque automovilístico español en nueve años de media

y su sustitución por catorce millónes de vehículos de los que más de tres millónes serán electrificados y cerca de cuatro millónes híbridos convencionales esa estrategia unida a los cambios en los modelos de uso de los vehículos permitirá según cálculos de la entidad

incluso por encima de los objetivos que recoge el plan nacional integrado de energía y clima anfac por tanto considera que un objetivo razonable sería el cincuenta por ciento

necesitamos hacer fuertes inversiones para ponernos al día coordinadas por un plan riguroso y ambicioso que garantice su coherencia

de un sistema de transporte integrado coordinado y sin duplicidades e ineficiencias de manera que el transporte en la comunidad autónoma de euskadi resulte como un sistema único fomentando a su vez sistemas de transportes innovadores avanzados

de costes sus objetivos son claros contribuir a la mejora del medio ambiente y la seguridad y salud de la ciudadanía reduciendo la contaminación atmosférica y acústica

la movilidad activa a través del uso del transporte público

proporcionar una oferta de transporte público que garantice la accesibilidad universal impulsar el equilibrio territorial de la comunidad autónoma de euskadi y la competitividad de su tejido económico mediante una red de infraestructura de transporte

potenciar la intermodalidad en el transporte de personas y mercancías a partir de una red de transporte público y de centros logísticos integrada y coordinada introducir los medios informáticos telemáticos y las nuevas tecnologías en general en la gestión del transporte y de la movilidad sostenible tanto

articular un sistema de relación interadministrativa organizado mediante un método de planificación estructural como se puede apreciar el texto hace especial hincapié en sentar las bases para un cambio en el modelo de movilidad basado en el uso de energías renovables entre las que se encuentra por supuesto la energía eléctrica pero sin ceñirse de forma exclusiva a la misma a efectos de promover todas las alternativas posibles que permitan

del sector del transporte en su conjunto aunque evidentemente somos muy conscientes de que el uso de energía eléctrica de energía eléctrica que provenga

fundamental para dar un salto cualitativo en el modelo de transporte

sostenible vemos necesario entre otros aspectos sin duda generar una reflexión en torno al modelo de movilidad de personas y de mercancías

un modelo de transporte basado en una alternativa pública compartida tal y como se está haciendo a través del diálogo con agentes y expertos en relación al anteproyecto de ley de movilidad sostenible

los vehículos eléctricos sin duda son parte imprescindible de ese nuevo modelo de movilidad es el futuro y no podemos ser ajeno a ello y desde el gobierno se está apostando por ello como el nuevo plan pime que debe plantear sin duda como objetivo el incremento progresivo el porcentaje de turismos

vehículos para que a ser posible en el año dos mil treinta al menos

para ello coincidimos en que resulta clave generar una hoja de ruta de medidas y objetivos y un cronograma con hitos de evaluación intermedia para el impulso de la venta de este tipo de vehículos y el despliegue de la red de carga pública al

vemos imprescindible que en dicho plan se recojan los objetivos que plantea esta enmienda

nacionalistas vascos y socialistas vascos apuesta por la sostenibilidad por el uso de energías renovables en el transporte por una movilidad eficiente y racional equilibrada eficaz

por un modelo de futuro eskerrik asko eskerrik asko

argitaratua euskadiko mugikortasun jasangarriaren lege aurreproiektua y por otro lado tenemos la estrategia energética de euskadi dos mil treinta que en su línea estratégica

y cómo uno fomentando la movilidad sostenible y la utilización de modos de transporte más eficientes dos promoviendo el uso del vehículo más eficiente y la utilización eficiente de los mismos y tres impulsando el uso de combustibles y tecnologías alternativas egia da

datos anteriores a la pandemia se espera que la población urbana aumente del setenta y tres por ciento en dos mil catorce a más del

las ciudades albergan más del setenta por ciento de la población actual de la unión europea y representan alrededor del ochenta y cinco por ciento del pib de la unión

a cabo todas estas iniciativas la colaboración interinstitucional será fundamental

el acuerdo que hemos alcanzado hoy es un gran paso para el compromiso para seguir transformando euskadi para que nuestras calles plazas barrios sean cada vez más limpias menos contaminadas

todos y todas instituciones empresas sociedad tenemos que cambiar hábitos y prácticas para llegar a una movilidad más sostenible eta amaitzeko

buenos días volvemos a hablar de una cuestión muy relevante para el país

cómo hacer concitar lo que es a día de hoy un sector estratégico para euskadi como es el sector del automóvil con la sostenibilidad y con

la necesidad de hacer coincidir un modelo de movilidad más sostenible que el que tenemos y que en las últimas décadas

en el país además de por su vertiente funcional obviamente también en este país supone

en relación con el empleo fundamental y por eso la transición que tenga que darse en relación con el modelo de movilidad que se dé en el país tendrá muchas implicaciones en términos laborales y fundamentalmente que para nosotros es también igualmente importante

en su modelo ecológico y de transición y desarrollo sostenible en cualquier caso y en relación con este debate

también se produjo un debate en relación con esta cuestión hace unas semanas hay

en procesos u objetivos a corto básicamente porque de cara

privado nos encontramos con obvias limitaciones que tienen que ver con la escasez

y materiales claves para su propia producción como se decía así como para su mantenimiento en el tiempo y por tanto y de ahí vino la reflexión que hace unas semanas hicimos en relación con la gigafactoría es obvio decir que

modelo que se persigue es sustituir los vehículos privados de combustión por vehículos eléctricos sino que obviamente tenemos que ir a un escenario en el que la reducción

se dé igualmente y que en ese sentido vayamos hacia un cambio de modelo integral en el que lo que impere progresivamente sea un modelo de alternativa pública y compartida como se refleja en el primer punto de la transacción de ahí que nosotros finalmente y nosotras vayamos a votar favorablemente a la iniciativa transaccionada porque creemos que en lo que

la parte sustancial de lo que debiese ser el objetivo a largo plazo en nuestro país y es

colectivo y público y es verdad que y en ese segundo punto se menciona tenemos que ir progresivamente para alcanzar ese objetivo

y la única alternativa a día de hoy por el modelo en el que nos encontramos

baterías eléctricas pero creemos ya digo e insisto en que esta no será la solución a largo plazo sino básicamente un elemento en transición

en el punto uno de la transaccional que es el de la movilidad colectiva

y pública y luego en el tercero de los puntos de la transaccional se hacen menciones a determinadas iniciativas concretas que en principio nos parecen adecuadas son ejemplos que se han venido desarrollando ya en muchas ciudades y en muchos países también aunque es verdad que hay

una cierta contradicción fruto de lo que yo decía respecto a esta reflexión inicial y es que aunque el objetivo

en el tránsito tenemos que ir hacia que el vehículo privado de combustión pase al eléctrico

se habla de subvencionar el paso al coche eléctrico y a su vez se dice en uno de los terceros puntos de ese

objetivo que se plantea en la transaccional ir tendiendo a menos en el

en la percepción de que el coche tiene que estar en el centro de la movilidad en cualquier caso creemos que es un buen acuerdo en términos generales pero sí que no podemos dejar de lado lo que el señor gil también ha mencionado y que nos parece importante y es que

transición del sector de la automoción es decir que creemos que

además creemos que algunos de ellos están caducos y que en ese sentido debiesemos de ir hacia un proceso de reflexión mucho más amplio que nos permitiese

en el seno de la elaboración de ese plan que creemos que debiese también tenerse ese debate en el seno del parlamento en cualquier caso creemos que es una buena noticia sobre todo en lo que se refiere al primer punto

marca el horizonte que para nuestro grupo parlamentario debiese ser el objetivo fundamental que es reducir las necesidades de movilidad de personas y mercancías e ir hacia el transporte colectivo

básicamente porque encima la enmienda a la totalidad inicial de los grupos que sostenían al gobierno poco se parecía

luego pasaron parece por lo que ha dicho hoy pasan a ayuso porque eso de a mí cómo me a decir nadie cómo me tengo que mover o dónde me tomo un pote o no sé las cervezas que me tomo no macron macron ha dicho

porque es absolutamente un disparate y un mal gasto de energía inasumible

ni no dejarla moverla es aplicar la racionalidad a las políticas

que todo el mundo es consciente de que la hipertrofia de las cadenas de valor globales nos han llevado a situaciones kafkianas como que haya una pandemia y no tengamos mascarillas

y un contrato precario tenga que desatascarlo porque si no el mundo se paraliza ahí es lo que hablamos de reducir las necesidades de movilidad y en cuanto a las personas estamos hablando

en la que en quince minutos uno se pueda desplazar y para eso no necesite un coche

y por supuesto todo esto tiene que hacerse con criterios políticos porque si hay uno hay muchos pero si hay un ejemplo claro del fracaso empírico de la autorregulación del mercado es el tema del cambio climático al cual nos ha traído el mercado supuestamente autorregulado y sin unas decisiones políticas muy determinadas

al calentamiento global al derretimiento de los polos y todavía espérate estamos intentando pararlo pero

europako mailekin parekatzea europa ha dicho que quiere treinta millónes de coches eléctricos en el año dos mil treinta lo que significa un coche por cada quince habitantes y eso significaría ciento cuarenta y cinco mil aquí actualmente se venden

antes de la crisis treinta y cinco cuarentazero no creo que haya que intentar volver a esos parámetros pero en parámetros de treinta mil coches al año en diez años que nos quedan

en el año dos mil treinta nos sitúe en el setenta y cinco por ciento que inicialmente pedíamos pero es que es más

que los térmicos lo que va a hacer es multiplicar exponencialmente junto con el desarrollo de otras tecnologías la extensión de estos de este tipo de modelos a los cuales nos queda dar un impulso en estos cinco primeros años y una última cuestión

entiendo que el pnv considera que son la mayor contribución al cambio climático que hay en este país pero yo creo que por ejemplo las campañas de propaganda del gobierno o los coches que llevan los consejeros que aunque sean híbridos pesan dos toneladas y media pues en términos de emisiones son mucho más contaminantes que las cartulinas que la mayoría son recicladas eskerrik asko

gracias señora presidenta nosotros no estamos de acuerdo en demonizar el uso del coche privado

y ni siquiera el de combustión que es verdad que tienen esos inconvenientes que usted ha mencionado

y nos facilita mucho la vida a todos no vayamos a defender aquí la vuelta efectivamente a esos coches

para la compra de vehículos privados que utilicen combustibles fósiles porque hay muchos trabajadores autónomos y empresas

y que no pueden permitirse hoy la compra de coches eléctricos por tanto eliminar esas ayudas significaría dificultarles sustancialmente su actividad laboral

la transacción haya desaparecido esa parte dicho esto

en todo el territorio y para eso hay que hacer fuertes inversiones aprovechando los fondos

y el fomento de la infraestructura de recarga inteligente de los vehículos eléctricos en los aparcamientos de los edificios de viviendas

como el plan renove permitiendo la sustitución de los vehículos viejos por otros menos contaminantes pero sin excluir a los vehículos diesel y gasolina es

que tenemos que realizar una evaluación de los objetivos definidos en el plan integral de movilidad eléctrica anterior

y actualizar este plan como ya hemos dicho casi todos para dos mil treinta

y fechas de realización de las mismas y presentarlo en el parlamento para su debate

no tiene ningún compromiso concreto es un conjunto de buenas intenciones pero se queda

ni hay nada de nada entonces claro me temo que es decir yo no sé si

y que efectivamente nos ha llevado a una situación en la que estamos cada vez peor

de europa es decir a la vista de los datos es imprescindible que haya una apuesta decidida que intensifiquemos las inversiones en este tema para reducir la distancia con las comunidades autónomas y con el resto de países europeos y aunque está muy bien que el gobierno apele a los cambios de los hábitos de los ciudadanos a ver si va a ser ahora culpa de ellos

la capacidad y la responsabilidad de hacer y de no hacer es del gobierno y en este sentido en este tema sí que

echamos de menos un claro liderazgo y una apuesta decidida

tenemos que decir que no estamos viendo muchas gracias eskerrik asko gil jauna euskal sozialistak andueza jauna bertatik zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea labur laburrean por contestar al señor gil vegas que en su primera intervención de alguna manera ha puesto

de movimiento a aquellas personas o imponer una serie de premisas para su movilidad nada más lejos nosotros no somos nadie para decirle a ninguna persona cómo

para moverse nuestra opción lógicamente es que esas alternativas sean eficientes sean sostenibles dar la posibilidad de que el transporte público les ofrezca alternativas que sean eficientes pues para que sean lo suficientemente atractivas y sostenibles para evitar que se use

más eficiencia en el transporte público y sobre todo una apuesta para que ese transporte público y cualquier

privado esté basado en el uso de energías renovables y para terminar eskertu eh bilduri uste dut bai alderdi sozialistak bai

no sé si no me ha escuchado mi primera intervención yo he dicho que hay dos vertientes

es muy importante casanova jauna un pequeño granito de arena por parte de cada uno es un gran paso en este tema creo que no es para menospreciarlo

y pensamos que es posible que no es ninguna utopía no tenemos que mirar más que a nuestras capitales para comprobar

se apuesta por el transporte público o se dispara el uso de la bicicleta

que reducen la contaminación y que mejoran nuestro bienestar y quieren frenar el cochecentrismo

poder llevar adelante esta transformación y algo muy importante

con todo lo que implica la movilidad verde la movilidad sostenible eta amaitzeko

hoy traemos una moción a esta cámara porque pasajes

de euskadi después del de bilbao de interés nacional también tiene gran importancia en el transporte de vehículos las fábricas de automóviles situadas en el interior como mercedes de vitoria volkswagen de pamplona se sirven del puerto gipuzkoano para dar salida a su producción

en la ciudad pero el caso que nos trae hoy aquí es la dificultad de expansión que tienen los vecinos de pasaia a la altura de la estación de tren de la antigua nacional uno ahora se llama gi seiscientos treinta y seis y el puerto

ante tantas instalaciones de interés nacional en un espacio tan reducido queda muy poco o nada para los vecinos pasajes llegó a tener veintiuno mil habitantes ahora tiene los mismos

habitantes y habrá muchas razones pero cuando los demás crecen

y no será una lectura justa para la ciudad si lo hacemos estrictamente en este concepto pero ayudaría mucho tener

en la que se da especial atención a la calidad de vida de los ciudadanos parques zonas verdes zonas para hacer ejercicio

se trata de ganar calidad de vida los pasaitarras tienen la oportunidad de recuperar terrenos de adif para su uso y su disfrute de esto va la moción que hoy presentamos de los ciudadanos de pasaia

gipuzkoanos sin tener el peligro que conlleva tener la nacional

nada más salir de casa y esto tiene un difícil encaje para los peatones las bicis

la situación es muy complicada para tener una calidad de vida para tener esas ciudades amables que tanto se prodigan hoy en día

estas son las casas y aquí tenemos la gi

y la playa de vías fíjense qué poco espacio tiene el carril bici peatones bueno todos se amontonan aquí

oculto es una ciudad que tiene gran valor por su ubicación estratégica sin embargo también es cierto que tenemos que hacer las ciudades amables para que las personas puedan

y hoy en día pedimos y es que

contempla un ensanche en el punto que les acabo de enseñar lo dije la semana pasada en este punto contempla un ensanche

y generando un espacio de desahogo para los vecinos y lo que nos acucia hoy en día es la necesidad de no hipotecar

queremos y siete años es porque es el plazo en el que se supone que estará tramitado o finalizado

queremos que hoy de este debate salgamos diciendo que hemos hecho todo lo posible

de pasajes tenga un futuro de calidad para sus vecinos y hablo de calidad porque la calidad de vida es muy importante el miedo que tienen

de remodelación de la estación de tren tal cual en la ubicación en la que está actualmente y

pero que se hipoteque a no volver a no plantearse

pide el ptp a su paso por la ciudad de pasajes por el hecho de haber hecho una inversión a día de hoy

si se podría mejorar la estación sin tener que llegar a rehacerla teniendo en cuenta que es importante que la estación de tren en las circunstancias en las que está reúna los requisitos de accesibilidad necesarios y acordes a lo que se tiene que cumplir hoy en día sería

esta oportunidad y otra de las cosas que quiero decir es

los ciudadanos trabajamos para darles una salida a sus problemas que nos pongamos de acuerdo y hoy tengo que decir que gracias a todos los partidos que se han puesto en contacto conmigo

que puede ser votada por todos los partidos en la que he tenido en cuenta todas las enmiendas propuestas todas las enmiendas que me habían propuesto para hacer

pudiera ser acorde a las exigencias que teníamos todos los partidos

de los vecinos de pasajes tengo que decir que lo más importante que puede hacer alguien en política es escuchar

de los ciudadanos y en este punto cuando uno

esa antigua nacional uno tengo que decir que es normal su reivindicación y entiendo que en estos momentos

un ensanche en esa zona tan deprimida tengan miedo y que nos hagan llegar su miedo de que puede que hipotequemos su vida

realizado la inversión y esto es lo que nosotros no podemos permitir porque una persona pues la esperanza de vida son unos setenta y dos años más o menos

cerca de casa les he enseñado la foto antes es que las casas están al pie de las vías

quieren recuperar el espacio para vivir la ciudad y nosotros tenemos la obligación de compaginar

la obligación moral de ponernos de acuerdo de coordinarnos con todas las administraciones competentes tal cual el ayuntamiento

y decirles por favor vamos a trabajar vamos a intentar buscar una opción vamos a intentar despoblar esas vías

llevando quizás el aparcamiento de trenes pues ahora exactamente en este momento no se puede llevar a irún como estaba antes por el tema de las obras que se están realizando

se puede contemplar otro tipo de situaciones que hagan que la ciudad de pasajes sea más ciudad mucho más amable de lo que es ahora tenemos la oportunidad y de esto se trata

se trata de dar soluciones y calidad de vida gracias eskerrik asko larrea andrea

algunas propuestas de soterramientos ferroviarios se suele decir que el coste que tienen en comparación con su beneficio social

y de gasteiz más adelante pero en este caso lo que se propone aquí no tiene nada que ver con eso

y creemos que absolutamente lógica y es la de aprovechar la idea que tiene adif de invertir tres millónes de euros para reconstruir

la estación que opera renfe que es de adif moviéndola hacia el norte hacia el puerto de manera que así la avenida de navarra de pasai antxo se pueda ensanchar y los antxotarras ganen en calidad de vida porque la boulevarización de dicho espacio

hiritarrei borroka hauek gauzatzen un reconocimiento a muchos y muchas

que llevan años luchando por una mejor integración del conjunto de las actividades y de los usos de los suelos existentes en pasaia

con el propio puerto con un objetivo además muy claro en un pueblo denso y con mucho terreno ocupado para actividades económicas con un objetivo muy claro que es mejorar la calidad de vida en pasaia

mejorar la vida de las pasaitarras no es un tema fácil aunque se pueda presentar

muy complejo pero no es imposible de realizar lo que se está pidiendo en esta proposición y por eso nos pareció pertinente la propuesta inicial aunque teníamos visiones

sobre el tema por eso presentamos esa enmienda

firmado porque se nos ha quedado algo corto para lo que podíamos llegar porque no se ha acordado

unos pequeños pasos que no están mal pero que se han quedado cortos

lo reitero con una playa de vías en pasai antxo en antxo preparadas seguramente para

nuestra actualidad y se va a proceder se está procediendo el proceso de renovación de la propia estación de cercanías que se ha citado por ejemplo por el señor

los propios miembros del equipo de gobierno municipal también se señalaban en esa moción que eso era impepinable la realización

de accesibilidad además

lugares de pasaia y de la bahía de pasaia el ptp recomienda ganar esos metros para la

esos metros para uso público y

y también en la pasada legislatura este propio parlamento en las recomendaciones que se aprobaron en la

también se hacía referencia al uso de los suelos y también en el plan estratégico comarcal también está señalada esa revitalización de los usos si se puede utilizar esta palabra baldíos de los terrenos baldíos de pasaia

en términos históricos que son entre seis y siete

variante por lo que el tráfico que pasa actualmente por pasaia también va a verse modificado por eso pensábamos que era un buen momento para más allá de esperar qué es lo que desde adif se propone esperar a que eso se produzca

para pensar qué hacemos en pasaia pues instar

a dialogar y a acordar una solución para que se pueda liberar el máximo espacio posible en la zona de la actual estación esto queda de forma

en la transacción que se ha llegado insisto que vamos a apoyar pero pensábamos que se podía poner el objetivo

en liberar espacio en pasaia tal y como todos los informes y propuestas que he señalado anteriormente también

la remodelación de la estación de renfe tenga en cuenta estas circunstancias

las obras pedimos planificar y coordinar como siempre se va a utilizar

vayamos anticipándonos a que si el uso de esas vías se vaya a cambiar pues bueno que vayamos planificando lo que va a ser el futuro de esa

pero que lo real porque no podemos ir con este acuerdo a decirles a los ciudadanos de pasaia que va a cambiar mañana la playa de vías que creo que ha sido quizás un poco triunfalista a la hora de vender el acuerdo y no es porque

por eso precisamente poner las bases planificar y coordinar para que cuando se produzca la situación de que

no haya que esperar más tiempo sino que se pueda realizar en el menor plazo posible y luego hemos introducido quizás es un debate adicional un tema que ya está aprobado en este parlamento pero que pues bueno los problemas con el puerto siguen

en esta iniciativa el conjunto de los terrenos que ya está previsto hace mucho tiempo que se ponga a disposición del ayuntamiento de pasaia se pongan de una vez por todas para poder desarrollar

izateko por lo que he comentado anteriormente bueno pues votaremos a favor de la iniciativa que

hoy debatimos sobre una moción relativa al ptp plan territorial parcial donostialdea bajo bidasoa

voy a negar la mayor señora larrea y es que la respuesta del gobierno la respuesta del consejero arriola fuera insuficiente la respuesta fue más que suficiente y adecuada no voy a reproducir lo que él dijo pero sí que me gustaría hacer alguna referencia

y fue tajante en su respuesta a las insinuaciones de la no puesta en práctica del ptp de pasaia y dijo que ni se esta maniobrando para evitar el desarrollo del ptp ni el plan se está incumpliendo por parte de ninguna entidad u organización y esta respuesta no puede ser más clara y tajante

nadie está en contra del proyecto todo lo que suponga creación de nuevos espacios o mayores zonas de esparcimiento para la ciudadanía debe ser bien valorado por cualquier administración así lo valoran todas las administraciones implicadas y así lo hace suyo el gobierno de hecho es el gobierno vasco el que ha aprobado el decreto que lo recoge como declaración genérica para este espacio y el grupo parlamentario socialistas vascos apoyamos

ahora bien la consecución de este objetivo no puede ni debe hipotecar actuaciones

ptp por lo que no se puede decir que no

consisten fundamentalmente y quiero repetirlas para que se sepa cuál es la magnitud de esas obras mejorar la accesibilidad y seguridad de la actual estación de pasaia construir un paso inferior entre andenes que dispondrá de ascensor

sustituir el viejo edificio de viajeros por uno nuevo que resuelva el desnivel existente entre el acceso y los andenes

se trata en definitiva de unas obras de adaptación de un espacio que presta un servicio público esencial a las necesidades actuales una obra que como decía no se debería despreciar porque esa

una mejora evidente en la calidad y las condiciones del servicio que oferta el operador ferroviario

e insisto en que estas obras hay que hacerlas porque son buenas para pasaia y para toda la ciudadanía y porque esto es lo urgente señora larrea renovar una estación

porque así se evitarán posibles accidentes ya que en este momento para pasar de un andén a otro hay que atravesar las vías en definitiva con estas obras se está primando y defendiendo el interés general y me tengo que referir también al acuerdo de gobierno entre mi partido el partido socialista de euskadi

con la apuesta que se hace en materia de infraestructuras y transporte sostenible las infraestructuras ferroviarias son de vital importancia para el municipio de pasaia

está experimentando un fuerte impulso que redundará en una mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos en los próximos años calidad de vida y soluciones actuaciones realizadas en consonancia con lo que en materia ferroviaria plantea el ptp de donostialdea bajo

el pasado mes de abril han sacado a licitación la construcción de la variante ferroviaria del topo entre altza

un proyecto dormido que lo han rescatado esta legislatura y que va a permitir incrementar las frecuencias de los trenes la nueva variante va a tener un

de una nueva estación subterránea y a ello hay que sumar la disminución de las molestias por ruido que el soterramiento de los trenes de viajeros va a suponer para los vecinos que viven cerca de la vía

así tienen previsto licitar este año un estudio de alternativas para

y gaintxurizketa lo que permitiría encontrar una solución al transporte de mercancías a su paso por antxo también están trabajando en la definición de la plataforma intermodal de lezo y el diseño de penetración

eliminar en el corto plazo una parte de la playa de vías de la estación y son que el futuro de la playa de vías de pasaia va ligado a la conexión de la alta velocidad para mercancías a través del ramal astigarraga lezo gaintxurizketa

tuvimos ocasión de escuchar la utilización de la playa de vías como aparcadero de mercancías y trenes para no interferir en el tráfico ferroviario de cercanías

y además la vinculación logística de esta playa de vías a la actividad portuaria que hoy por hoy pasa por

y es que en definitiva estamos hablando de una red ferroviaria de interés general también adif va a empezar en otoño la obra para la conexión ferroviaria entre lezo y el puerto de pasaia que permitiría la entrada de trenes más largos en la localidad

y calidad de vida pero estamos aquí para limar asperezas para acercar posturas y buscar coincidencias para intentar llegar a acuerdos por el bien de los pasaitarras y por el bien del interés general y eso se espera de nosotros y nosotras que representamos a la ciudadanía que nos ha votado y agradezco los esfuerzos de todos los grupos por llegar a un acuerdo ha sido posible con el grupo que ha presentado la moción populares vascos ciudadanos al que le agradecemos

la firma de una transaccional junto a nacionalistas vascos y por supuesto
mi grupo el grupo socialistas vascos nada más y muchas gracias eskerrik asko san josé andrea

hoy con la satisfacción de poder decir a los que forman parte de la plataforma nueva estación de tren de pasai antxo que tengo que reconocer que es cierto que la iniciativa de mi interpelación así como la moción de hoy viene

por ellos ellos se acercaron a todos los grupos de este parlamento nos hicieron llegar sus inquietudes

era que la remodelación de la estación tal cual estaba hoy por un anuncio que se había dado en prensa con tres millónes de euros podía hipotecar

el ensanche o la boulevarización de esa zona de pasai antxo

es que vamos a trasladar mediante esta transacción

del ptp en esa zona para poder conseguir

lo que va a conseguir es una ciudad pasai antxo más amable

preciosa que cuando podemos pasear por ella por las zonas de expansión que ya tiene es una ciudad

san pedro o sea hay un montón de zonas que visitar y es preciosa pero

es que unos vecinos se habían sentido desamparados porque consideraban

sus reclamaciones que habían conseguido un veinte por ciento de las firmas para que en pasaia se hiciera

vivir la ciudad de forma más amable y hoy puedo decir que hemos conseguido que todos los grupos que componen este parlamento puedan llegar a apoyar una iniciativa

estamos hablando de un plan territorial parcial estamos hablando de que el plan general de ordenación urbana en principio está en proceso

de participación para la elaboración del avance de dicho plan y junto a ello todas las actuaciones ferroviarias para poder

es difícil cuantificar en años porque en realidad yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en lo mismo en lo gordo pero el tema son cuántos años no hay cuestiones previas y mientras tanto lo que intentábamos hacer ver es que la estación

está prestando un servicio deficitario con unas necesidades de inversión en accesibilidad y adaptación y sí que dejar claro que no es

sino todo lo contrario la ejecución de las obras previstas por adif en la mejora de la estación pasai antxo y la voluntad de trabajar para la mejora e incorporación de nuevos espacios para el municipio y sí que quiero dejar claro que esta es la voluntad